crecen de forma consistente y se mantiene la creación de empleo ayer efectivamente tuvimos un nuevo indicador positivo

pero queda mucho por hacer y vamos a tener que seguir haciendo un gran esfuerzo para recuperar en el año dos mil veinte la posición previa a la crisis

apostar por la especialización inteligente en sectores de futuro

la clave es internacionalizar la economía para ganar capacidad en el mercado global disponer

contar con una fiscalidad que apoye la inversión productiva y la innovación

cualificada en la universidad y la formación profesional planes de empleo y primeras experiencias laborales para la juventud garantizar las condiciones de estabilidad y confianza que favorezcan la inversión y el desarrollo de la economía la clave es seguir creciendo décima a décima la evaluación del plan de empleo y reactivación económica dos mil catorce dos mil dieciséis acuerdo pnv partido socialista de euskadi muestra que a día de hoy el noventa y seis por ciento de las iniciativas están ejecutadas y los resultados superan el ciento diez por ciento así por ejemplo hemos alcanzado

la cota más elevada en cuatro años ahora toca crecer

es mantener la gobernabilidad apoyar la economía productiva garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas este esfuerzo compartido nos va a permitir mantener los servicios públicos y garantizar un país sostenible

en torno al veinticinco por ciento de la economía y crear empleo de calidad y reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento esta década

garantizar la gobernabilidad y la estabilidad nuestro apoyo a la economía tiene como objetivo conseguir una sociedad cohesionada y con calidad de vida

lehendakari podríamos hacer de este debate breve que tenemos por el tiempo una guerra de cifras

supongo que en un plural inclusivo pero no es verdad que todos estemos dejando y todas atrás la recesión porque hay medio millón de personas en este país que se encuentran en pobreza y riesgo de exclusión

ha señalado como un eje prioritario para usted cosas como un sistema de protección social único para no dejar a nadie atrás hay medio millón de nadies en este país que se tienen que quedar atrás porque esa es la realidad que tenemos y yo no dudo de su buena voluntad

a afear su compromiso con evitar que haya personas que estén en riesgo de pobreza exclusión lo que pongo en cuestión lo que confronto son sus políticas porque sus políticas no son políticas que eviten la dualización eviten la quiebra social que eviten que el presidente de iberdrola gane cuarenta y cuatro mil euros al día mientras la gente cada vez tiene más dificultades para hacer frente

esa es la realidad que vivimos una realidad que pasa de la crisis económica a la crisis social

en la oscuridad en la pobreza infantil en la miseria y en el hambre para que

los datos macroeconómicos así lo indican pero es un crecimiento empobrecedor es un crecimiento que beneficia a unos pocos en detrimento de una gran mayoría es un crecimiento que se basa en una optimización

porque es verdad que ha disminuido el desempleo pero se lo decía o lo decía ayer

y con contratos precarios esa es la realidad en la que estamos y por eso señalamos la preocupación que le he manifestado porque el diagnóstico de este país es que la realidad se impone a los deseos y en esa realidad vemos que las mujeres siguen cobrando una media de ocho mil euros menos que los hombres

alguna vemos que hay treinta y cinco por ciento de paro juvenil frente al diecisiete por ciento que hay en europa vemos que hay cien mil personas sin ningún tipo de prestación de entre los parados de entre los

conocidos ayer el sesenta y cuatro por ciento de los parados no recibe ninguna prestación

mientras que en europa es de nueve por ciento y en la eurozona es del diez por ciento yo no creo sinceramente que estemos para

alharacas yo creo que el riesgo de exclusión que el riesgo de pobreza cada vez es más extendido en la sociedad porque se están siguiendo patrones de conducta que no ayudan y yo le hago una última pregunta la ley de servicios sociales que el veinticinco de diciembre tendría que garantizar el derecho subjetivo al acceso

mahaiburu andrea señor matute para no haber querido entrar en guerra de cifras ha tenido usted una segunda intervención con una comparativa de cifras también con la unión europea

en mi intervención inicial ha sido que gastamos tres de cada cuatro euros en políticas sociales y

yo agradezco su reconocimiento al crecimiento de la economía

énfasis en la necesidad de seguir impulsando las políticas públicas mire he afirmado que solo habremos superado la crisis cuando logremos superar sus efectos

he afirmado que sí es preciso reforzar las políticas públicas pero también le tengo que decir que hoy euskadi dedica más inversión a educación sanidad y protección social que antes de la crisis más que en nuestro entorno y en sintonía con lo que se dedica en europa

la que sustenta este sistema de protección desde hace casi tres décadas esta cámara ante la profundidad de la crisis el sistema vasco de prestaciones ha jugado un papel decisivo y la política de garantía de ingresos ha permitido que la crisis no se traduzca en un incremento de las situaciones más graves de pobreza euskadi además forma parte del grupo reducido de países europeos que cuenta dentro de su política de garantía de ingresos con un sistema de estímulo al empleo que permite una mayor protección a la población ocupada con bajos salarios mire

reforzar las políticas públicas y lo vamos a hacer a través de un doble esfuerzo el esfuerzo por mantener un sistema de prestaciones

elemento contenedor de esa brecha social fundamentalmente ligada al desempleo

haciéndolo llegar a todas las personas necesitadas estamos revertiendo la situación estamos garantizando la cohesión nos corresponde seguir

que sigan siendo viables que sigan siendo viables y sostenibles eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako

telebista kate publiko bakarra pizten venimos alertando desde hace tiempo sobre lo que está pasando en la televisión pública y la respuesta del gobierno

y que no se debe cuestionar la gestión del ente público los socialistas no cuestionamos el servicio público de radiotelevisión cuestionamos a quienes los están llevando a la irrelevancia y a quienes lo consienten y los responsables de que hasta los chavales en su gran mayoría matriculados en euskera en sus escuelas

se escapen a cualquier otra cadena que no sea en euskera deberían asumir el fracaso

por poner un ejemplo y seguir con la programación infantil son muchas las cadenas temáticas que ofrecen series y dibujos como etb hiru

mientras doraemon en etb hiru sigue en el parvulario en otras cadenas está ya en la universidad

engainatu honetaz isiltasuna mesedez crear canales artificialmente para tratar de arañar décimas

es hacerse trampas al solitario la realidad nos muestra otra imagen en este mandato no se ha orientado la oferta de nuestra televisión a los intereses de quienes la pagan por lo tanto se han estado derrochando recursos públicos señor lehendakari menos gastar en encuestas electorales que es una labor que no corresponde a etb para ello tienen sobrados recursos y más calidad

somos conscientes de la situación y tratamos de acompañar a la dirección de e i te be para lograr el cambio

algunos aspectos les corresponden a los profesionales y otras cuestiones están en nuestra mano por ejemplo dotarle de una mayor estabilidad para que puedan impulsar su plan estratégico

que recoge los compromisos las actividades y los objetivos específicos a cumplir por e i te be y sus sociedades y señala también los compromisos del gobierno vasco para su financiación así como los mecanismos de control de ejecución así pues a este gobierno le corresponde poner a disposición de e i te be los medios financieros para su buen funcionamiento
y la obtención de un respaldo social y nos consta que están trabajando en ello eskerrik asko

sí señora consejera efectivamente no es la primera vez que hablamos de esto en el ecuador de la legislatura tuve este mismo debate con el lehendakari entonces discutíamos

pero es que hoy no llegamos ni de lejos al diez los datos de estos últimos días nos dicen que entre los cuatro canales de etb no llegan a nueve coma cinco

que e i te be dos registró en mayo el resultado más bajo de su historia

a la dirección del señor surio se le machaco por parte del grupo que apoya a su gobierno con las audiencias pues bien entonces

hoy con cuatro no se llega a los peores datos de la anterior legislatura en el debate al que me he referido el lehendakari argumentaba como usted lo ha hecho hoy también

había bajado un doce por ciento ocurre que entre los presupuestos dos mil quince y dos mil dieciséis el incremento ha sido del seis coma cincuenta y seis por ciento y el resultado

por dar otro dato hoy cada vasco y vasca contribuimos con tres euros más que en dos mil catorce para e i te be exactamente nos sale a cincuenta y dos euros por cada vasco y vasca y esto es lo que nos parece más grave que el dinero de la ciudadanía no se gestione correctamente

creo que esta situación debería inducir al gobierno a actuar a exigir respuestas

la de mirar hacia otro lado y un apoyo acrítico a una dirección que no está respondiendo al reto que tiene que afrontar estas reflexiones no se hacen se siguen contratando a las mismas

que siguen fabricando programas que siguen fracasando y no fracasas porque este parlamento

se trata de aceptar la realidad tal y como es y actuar en consecuencia

escenario que se debe en buena medida al cambio de modelo televisivo promovido desde el gobierno central con leyes y medidas

flaco favor se hizo entonces a eso sumaria además la actuación interesada de algunos partidos políticos ejerciendo una presión que nada ayuda a los intereses de e i te be

la crisis económica ha conllevado una importante disminución de ingresos tanto públicos como privados eta kirol esparruari begiratzen badiogu kirol eskubideen elkartearekin

datu guztiak ez dira kritikagarriak ezta gutxiago ere etb mantiene la segunda posición en el ranking de televisiones autonómicas

desde hace mucho tiempo etib radio tiene una cuota de mercado de casi el cuarenta por ciento un caso único y singular en el modelo público que supera la barrera de los quinientos mil oyentes

e i te be net también cerró el año pasado batiendo records a punto de alcanzar los dos millónes de usuarios únicos al mes y más de cien mil usuarios nuevos que acceden regularmente a e i te beeus denon eskuetan

buenos días señor lehendakari no es la primera vez que en este parlamento se pone en evidencia el uso político que el gobierno vasco y el pnv

a lo largo de su trayectoria las decisiones que se han tomado en e i te be

primero de todo a criterios políticos del pnv a razones partidistas ese control político esa utilización política esa burda instrumentalización política probablemente

y esa sí debería ser la preocupación de quienes han estado en la dirección de e i te be en los últimos años una televisión pública con unas funciones bien definidas con una dotación presupuestaria considerable

esa es la fotografía real de la televisión y de la radio pública vasca hoy en día que por desgracia difiere poco de la que lleva siendo desde su creación

de los profesionales que trabajan en e i te be a quienes respetamos mucho más que ustedes pero que a estas alturas saben de sobra quién manda y quién decide en esa casa y con qué criterios que desde luego nada tienen que ver con los profesionales a los profesionales de e i te be se les lleva menospreciando muchos años hasta poner a muchos de ellos de patitas en la calle

que suponen un gasto cuantioso y realizando trabajos que les correspondería a ellos salvo en contadas ocasiones

siempre se han impuesto a las decisiones y a los criterios profesionales la función de servicio público de e i te be ha estado al servicio de las conveniencias políticas del pnv y el resultado es que tenemos hoy una televisión pública que cuesta mucho dinero que está claramente alineada con los posicionamientos del pnv

porque lo político el interés político del pnv siempre se ha impuesto a cualquier cuestión profesional

la última e i te be contratando estudios demoscópicos y haciendo de la proyección de sus resultados un baluarte de su programación en las últimas semanas

señor lehendakari que la televisión pública vasca se gaste semejante dinero en encuestas qué sentido tiene que la televisión pública vasca contrate con empresas

cuando el gobierno vasco dispone de instrumentos que ya realizan estos trabajos le parece a usted decente que la televisión pública se gaste dinero en encuestas y al mismo tiempo esté despidiendo personal

cuáles son las razones profesionales que justifican estas encuestas eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakari jauna

señora llanos dejó para otra ocasión lo que pueda ser el debate sobre lo qué es uso político criterios políticos control político e instrumentalización política

desde su creación sin criterio profesionales contratando productoras externas

dejó para otra ocasión el debate cuando podamos hacerlo también en relación a lo qué fue la legislatura pasada en la que ustedes tenían también responsabilidad de gobierno y también supongo que en lo que pudiera ser el contrato de productoras externas etcétera etcétera que usted ha dicho en su acusación al partido nacionalista vasco en todo caso dicho lo que pregunta señora llanos los criterios para poner en marcha esta iniciativa han sido dados a conocer por la propia e i te be ofrecer una información de proximidad poner el foco en cuestiones de actualidad y profundizar en la opinión pública sobre temas sociales como la educación las relaciones con los hijos e hijas en la familia o la economía doméstica en euskadi

mire son habituales en todos los medios de comunicación y de hecho solo desde las elecciones del veinte de diciembre pasado se han publicado al menos cuarenta encuestas diferentes y todas estas encuestas se han difundido con gran profusión en los medios de comunicación también en euskadi y muchas han sido encargadas por los propios medios

y den a conocer estas encuestas y tiene lógica que también e i te be pueda hacerlo beraz euzko jaurlaritzak ez du parte hartzen eitbko

señor urkullu no nos engañemos no responde a un interés de e i te be el pnv

por los próximos resultados electorales y todo apunta a que una vez más el pnv ha decidido utilizar a e i te be en beneficio propio como lanzadera de prospección sociológica haciendo un trabajo que le correspondería pagar al partido nacionalista vasco de su propio bolsillo y haciendo una utilización interesada de la encuesta porque el valor

que se den a esos datos y desde luego e i te be está haciendo un uso interesado de la encuesta y siempre a favor del partido nacionalista vasco usted hablaba de dinero acaso está sobrado e i te be de recursos económicos

porque había dificultades económicas o qué pueden pensar cuando hay una sentencia que tienen que cumplir para devolverle el cinco por ciento y sin embargo no se cumple por falta de recursos económicos de verdad usted cree que entre las funciones de e i te be está realizar encuestas no

son decisiones caprichosas interesadas y suponen dinero que cuesta a todos los vascos y supone un desprestigio para la propia e i te be y agrandar la dolosa que cuenta desde su creación
páguense la campaña con su dinero no utilicen a e i te be como soporte de estrategia porque además de caro es intolerable eskerrik asko llanos anderea lehendakari jauna zurea da hitza

lo que realmente creo que le molesta son los resultados de las encuestas no las encuestas sino los resultados de las encuestas mire esta es una iniciativa de e i te be

que aportara una visión de mayor proximidad centrada en la perspectiva social y política de la sociedad vasca y este es el origen de esta iniciativa focus e i te be

si usted cree que e i te be funciona como ha podido funcionar o pueda funcionar televisión española

pues mire no el despliegue que usted cita de que este estudio se haya dado a conocer a través de todos los medios del grupo de e i te be es en realidad la mejor prueba de su interés informativo

usted cuenta con representación en el consejo de administración y también en la comisión de seguimiento y control de e i te be en este parlamento vasco y en estos órganos puede usted solicitar y obtener toda la información relativa a esta iniciativa focus e i te be puede plantear

gracias presidenta buenos días señor lehendakari hace aproximadamente dos años denunciamos políticamente la utilización de dinero público por parte del gobierno vasco para beneficiar a medios de comunicación afines al partido nacionalista vasco y para comprar noticias se llegó incluso a pagar a determinados medios de comunicación

en cualquier democracia el gobierno vasco negó inicialmente los hechos nosotros lo que hicimos fue presentar una querella una denuncia ante la justicia los delitos

extraordinariamente graves estamos hablando de malversación de caudales públicos de fraude a las administraciones públicas y de prevaricación se produce entonces la primera

del director de comunicación del gobierno vasco cuál es la reacción del gobierno vasco ante esta primera imputación lo que hace es recolocarlo en otro lugar del gobierno vasco lo cual

insulto a la ciudadanía se producen más diligencias se producen más imputaciones la próxima cita está señalada para el día veinte de junio dos nuevos imputados del gobierno vasco seis personas ya acusadas

investigadas por la supuesta compra de noticias a medios de comunicación afines utilización de dinero público por lo tanto en beneficio del propio gobierno extraordinariamente graves que están siendo investigados qué opinión le merece señor lehendakari todos estos hechos reconocen los hechos han aprendido algo van a pedir perdón van a colaborar con la justicia

van a recolocar como hicieron con el primero de ellos cómo van a reaccionar qué lecciones han aprendido van a seguir riéndose de los ciudadanos ante estos hechos

su pregunta versa sobre la opinión que merece al gobierno vasco el trabajo que está desarrollando un juzgado de instrucción en relación con una querella que presentó usted

esa causa como usted bien sabe tiene origen en un debate parlamentario que usted judicializó

pero este gobierno no es partidario de hacer lecturas políticas de actuaciones judiciales y menos aún cuando se encuentran todavía una fase tan preliminar como esta porque puede tener sentido valorar una sentencia pero carece en absoluto de sentido

unas diligencias previas que es la fase en la que se encuentra esta causa en este momento la titular del juzgado al que usted ha hecho referencia está haciendo exactamente lo que tiene que hacer un juzgado de instrucción cuando se le presenta una querella ni más

lo mismo que están haciendo cientos de juzgados de instrucción todos los días en innumerables partidos judiciales de todo el estado español y este gobierno

como no puede ser de otra manera colabora con ellos como es en este caso cada vez que es requerido para ello y lo que no hace es someterlos al escrutinio público ni someternos a debate público respeta la actuación de los jueces colabora con ellos en todo lo aquello en lo que les es requerido y espera sus pronunciamientos para después en su caso

el lehendakari tiene miedo a responder porque es un hecho evidentemente

y no sabemos cómo va a acabar igual acaban siendo ustedes todos imputados por la compra de noticias esta querella de upyd no tiene su origen en un debate parlamentario tiene su origen en la evidencia de que el gobierno vasco ha retraído dinero público comprar noticias y para subvencionar a medios de comunicación afines ese es el origen de la querella no un debate parlamentario porque debates parlamentarios hay todos los días

varios delitos muy graves y por lo tanto presentamos la querella esto es lo que ha hecho upyd ustedes cuando se produjo la primera imputación

cambiar de puesto a esta persona imputada esto es una vergüenza y un insulto a los ciudadanos cambiar de puesto para tratar de engañar a la opinión pública

no van a hacer absolutamente nada no van a cesarlos yo les pido que los cesen porque están siendo investigados por una vulneración de la legalidad vigente

ahora mismo la causa ha sido declarada como de especial complejidad con lo cual

que durarán en fin meses qué ocurrirá si alguno de ustedes acaba siendo imputado señor erkoreka porque no están colaborando con la justicia no están colaborando como debieran con la justicia se pasan la patata caliente

y así pasa el asunto de un miembro del gobierno a otro miembro del gobierno vasco hasta que les toque a ustedes y ustedes deberían dar la cara reconocer los hechos pedir perdón y colaborar con la justicia esta querella ya digo no

maneiro usted tiene una versión una versión que ha llevado a los jueces que ha reflejado en su querella y que espera que la justicia la coja claro la pregunta a partir de ese momento es una vez que usted ha presentado esa querella

en la órbita judicial usted espera que la justicia avale su tesis su versión de los hechos

no le gusta cómo está llevando a cabo la instrucción sospecha de ella

quiere que los titulares de los medios de comunicación acojan una tesis que ejerce

usted pregunta si considera el gobierno que hemos cumplido que se ha cumplido la ley de publicidad institucional siempre ha considerado que ha operado con una interpretación posible de entre las posibles de la ley de publicidad institucional exactamente igual que lo están haciendo muchas otras administraciones

usted debería saberlo no es ese el problema en este caso usted ha optado por la jurisdicción penal es si se ha vulnerado o no no esa ley sino las normas jurídico penales que es otra cuestión usted pregunta sobre los imputados los imputados han hecho todos una consulta a la comisión ética y hay pronunciamientos expresos de la comisión ética en relación con todos

por tanto hay una posición que yo creo que responde claramente a su pregunta señor maneiro algún día traeremos aquí el listado de personas que usted ha condenado de esta tribuna

muchos de ellos después exculpados por los jueces y tribunales que han conocido de las causas a veces por absolución y en otros casos muchos también por sobreseimiento

impunemente a cientos de personas que después han sido exculpados por los jueces le puedo asegurar que no

muy positiva de usted como demócrata comprometido con la defensa de los derechos fundamentales eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako

el consumidor conectado a la red y acogido al autoconsumo se beneficia del respaldo que le da el sistema por lo tanto es razonable que pague por ese respaldo

español para poner un peaje de respaldo mal llamado de respaldo al autoconsumo es decir además de pagar el acceso a la red pagar un sobrecoste por estar utilizando placas solares y no estar utilizando la red

se puede considerar que estos peajes están concebidos de una lógica razonable razonable por qué y acaba diciendo va a dar como resultado hay que ser conscientes de que dado que normalmente la generación eléctrica en pequeñas instalaciones es más cara que en instalaciones centralizadas cara

volver a hacer una valoración de los costes de la energía sin tener en cuenta la variable medioambiental porque si tenemos la variable medioambiental en cuenta no sería más cara pero bueno dice el eve que es más cara en pequeñas instalaciones que en instalaciones centralizadoras la suma de unos peajes de respaldo superiores a los de acceso

va a dar como resultado un coste de la energía superior al actual por lo tanto dice que es lógico poner un coste de respaldo de respaldo y que eso va a encarecer el autoconsumo y ese es el informe que se manda a madrid eta hau da hori ez dugula onartzen zergatik esaten baduzue

gobierno vasco realizó dos alegaciones diferentes a sendas propuestas de reales decretos para regular el autoconsumo uno en el dos mil trece y otra en el dos mil quince

las alegaciones presentadas en el dos mil trece responden a un proyecto de real decreto por el que se establece la regulación

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo eso es lo que decía y se remitió a la secretaría de estado

dieciocho de julio de dos mil trece y a continuación se remitieron otras alegaciones diferentes en dos mil quince como respuesta a otro proyecto de real decreto por la secretaría de estado a la misma comisión con fecha dos de junio de dos mil dieciséis ambas alegaciones están absolutamente alineadas si bien si no analizamos lo que dice cada uno de los decretos si no analizamos

absolutamente discrepantes pero hay que leer los dos decretos y las dos situaciones para entender bien qué es lo que se dice en cada uno de los casos

pero creo que así fue y además como usted bien dice gure momentu honetan dagoen

neurriak izango direlako por tanto como gobierno vasco somos absolutamente partidarios de que los consumidores tanto particulares como

y que se produzca el autoconsumo sin trabas ni burocráticas ni impuestos adicionales eso que quede claro consideramos que el autoconsumo debe estar regulado por supuesto

deben pagar por la disponibilidad de la red eléctrica en determinados momentos cuando ellos no son capaces de llegar con su autoconsumo es decir

consideramos por tanto que debemos evitar todos los sobre costes que se produzcan

del caso del déficit tarifario que se dio como consecuencia de una mala regulación y una utilización descontrolada de la producción fotovoltaica en el estado español

está pagando y va a tener que pagar durante muchos años por tanto para evitar esa situación décimos en la medida que el auto consumidor se conecte a la red bien porque necesita energía o bien porque ha generado más debe pagar por esa situación tenemos que tener en cuenta que la estructura del peaje de acceso a terceros lo que es

en el momento en el que se hicieron las alegaciones de dos mil trece eran absolutamente diferentes a las de dos mil quince por qué porque el pago que debían hacer los autoconsumidores por conectarse a la red eléctrica se hacía en circunstancias absolutamente diferentes y me explico después de que se hiciera ese envió

nacional en julio de dos mil trece con fecha uno de agosto de dos mil trece también el gobierno por parte del gobierno vasco se hizo la alegación correspondiente pero se aprobó una orden por la que se revisan los peajes de acceso aplicable del tres de agosto de dos mil trece con esta orden se incrementó el término de potencia en los peajes de acceso y además se redujo el término de energía sé que son términos técnicos pero en definitiva el efecto neto de esta modificación significaba que para un consumidor medio el efecto

y para aquellos que realizaban autoconsumo pasaba a ser muy pequeño y era prácticamente igual que ensituación de aquellos que no generaban o que no eran autoconsumidores por tanto el autoconsumidor conectado a red en ese momento pasaba a disponer de la red en las mismas condiciones que cualquier otro que no realizaba autoconsumo no se encontraba penalizado es decir

se produce esta orden que modifica absolutamente la situación

hay que entenderlas en ese ámbito en julio del dos mil trece en agosto se pone en marcha este decreto

por tanto en esa situación y dado que el autoconsumidor pagaba vamos a decir lo que debe

a gastos adicionales puesto que ya la conexión a red vuelvo a insistir para casos de necesidad de energía o para emisión de esa energía excedente el peaje de acceso existe y consideramos que desde luego

y bajo ningún concepto se debe imponer un nuevo peaje denominado de respaldo o el que

y por ello tras la presentación del nuevo borrador de decreto en dos mil quince finalmente aprobado como real decreto novecientos barra dos mil quince el gobierno vasco solicitó

del mismo a través de un escrito dirigido a la comisión nacional de mercados y competencia por tanto cuando hablábamos de todas esas actuaciones y todas esas

consideramos que no hay que poner ninguna otra traba administrativa y por tanto solicitamos la inmediata retirada del decreto además de solicitar la retirada del decreto el grupo parlamentario del pnv firmó

que se desarrollara el autoconsumo eléctrico sin esos peajes y sin esa nueva situación

a esa proposición que se aprobó en este parlamento y por qué no se ha realizado txosten hori zergatik ez dugu egin sei hilabete hauetan

ezin dela egin por qué puesto que en este momento generaríamos una competencia diferente y la comisión de competencia automáticamente elevaría o generaría un recurso que nos impediría hacerlo

desde luego trabajando es que como desarrollo de esa estrategia energética pueda establecerse una normativa propia y una forma de autoconsumo que sea diferente y que nos permita regularlo sin
esos posibles recursos que se puedan interponer desde diversos órganos del estado eskerrik asko eskerrik asko tapia

lo que me ha querido usted explicar ha querido usted contextualizar en momentos diferentes que se hacen esas alegaciones

como un respaldo al sistema impositivo que hay hoy en día en marcha para el autoconsumo a nivel estatal es que yo leo independientemente que se hiciera en el dos mil trece y eso es cierto que todavía falta un desarrollo

pero que dice literalmente el eve decía

por lo tanto es razonable que pague por ese respaldo los peajes de respaldo van a frenar el desarrollo del autoconsumo respecto a la situación actual en la que están no existen sin embargo se puede considerar que estos peajes estén concebidos de una lógica razonable

sigue siendo apoyar el impuesto al sol apoyar que además de los peajes de acceso

eso va a haber que pagarlo el peaje de acceso hay que pagar un peaje de respaldo

de un peaje de respaldo que supone decirle a una persona que pone una placa que es un insolidario

que produce por carbón por gas por nucleares mientras él está produciendo de manera limpia hay un sistema que nos da servicio a todos que también hay que mantenerlo y como es insolidario tiene que pagar un plus por eso el peaje de respaldo y eso es lo que existe hoy en día y eso es lo que viene a decir el eve que es lógico y está bien no lo podemos entender y

de sus explicaciones pero es que además ha dicho también que si encima hay un balance neto que es positivo es decir que produzco con mi placa energía de autoconsumo pero en momentos determinados del día que

tengo que pagar pero por qué si estoy dando a la red desde luego que la red me da un servicio pero yo le estoy dando al sistema una energía limpia

acerca el lugar de producción de la energía o de generación de la energía con el del consumo y encima tengo que pagar más

ese vertido a la red se tenga que hacer de todas maneras con la legislación actual no hay balance neto se prohíbe directamente no es que tenga que pagar más por verter a la red es que se prohíbe encima

de respaldo esa es la situación y si ustedes dicen que están en contra del decreto del real decreto

tal y como está hoy en día en el estado español no es de recibo que hagan informes y mandan informes que digan que el peaje de respaldo tiene su lógica razonable y eso es a lo que queremos ir con esta interpelación y lo queremos primera parte y segunda parte se puede hacer una normativa que palie esa situación se está haciendo y hay comunidades autónomas que se están moviendo ha sido pionera murcia y lo hemos dicho pionera porque ha tenido ya un auto del tribunal constitucional avalando

qué es lo que ha hecho simplemente considerarlas aunque luego materialmente no sea real las ha considerado las placas solares como instalaciones aisladas para

de que se les aplique ese peaje y lo están haciendo y aquí qué hace seis meses hubo una propuesta no de ley que les pedía un informe precisamente para sabe qué posibilidades teníamos

el desarrollo de la estrategia energética suena a excusa suena a excusa

de respaldo se pueden hacer informes para ver cómo se puede saltar la legislación o saltar o por lo menos paliar los efectos de esa legislación y luego decirme que las que no pueden ustedes poner ayudas económicas

porque en estos momentos ha aumentado el coste de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo simplemente lo que se le pedía en aquella propuesta era que aumentaran esas ayudas no que digan exactamente que hacemos esto para no cumplir con el decreto

no hacemos informes para enviarlos al ministerio ni a la comisión nacional hacemos alegaciones a decretos que son cosas diferentes

cuando alguien hace autoconsumo tiene dos formas de hacerlo una tiene placas solares o mini eólica y tiene baterías con lo cual es un sistema aislado absolutamente o no lo es y en la mayoría de los casos no lo es y si no lo es cuando

esa persona que hace autoconsumo se tiene que conectar a la red porque en ese momento querrá electricidad digo yo luego tendrá que pagar por

cierto bien luego eso es lo que nosotros estamos diciendo que tiene que producirse

si se conecta a red para absorber energía en un momento en el que no está generando evidentemente tendrá que pagar por esa energía en ese determinado momento y sabremos cuantos kilovatios en qué condiciones

eso es respaldo respaldar el sistema que no es autónomo está claro en segundo lugar cuando a nuestro juicio si se genera más de lo que se consume hay que verter a la red y a nuestro juicio se puede verter por eso no estamos de acuerdo con el decreto entre otras cosas

una hay que pagar el acceso de esa energía a la red que ya existe y esa hay que abonarla como se abona en cualquier sitio otra cosa es que se puedan establecer cánones

a energías renovables y entonces la compañía eléctrica o la red

por esa energía que está produciendo por un medio renovable pero no confundamos las cosas son dos temas absolutamente diferentes uno es la conexión y otro es que canon establecemos como subvención porque usted está generando una energía renovable son dos cosas no las liemos dos cosas diferentes y seguimos pensando

personas que están ejerciendo un autoconsumo en un momento si necesitan el respaldo de la red porque no

y si están emitiendo o vertiendo a la red más energía porque no la consumen absolutamente evidentemente también tiene que abonar otra cosa es

energías renovables son cosas absolutamente diferentes y estamos a favor de todas y cada una de ellas y digo que el decreto de dos mil quince en este momento está

eso no significa que nosotros no vayamos a establecer una nueva legislación que no esas ayudas las que usted está hablando porque evidentemente en otras ocasiones ustedes

nos dicen que tenemos que ser absolutamente rigurosos con todas las ayudas y todos los decretos de ayudas que establezcamos y ahora usted me dice que lo haga de aquella manera que haga trampas

somos legales transparentes y rigurosos o solo cuando nos conviene pues este gobierno va a ser riguroso transparente y absolutamente leal con lo que está haciendo siempre y en este caso también lo va a ser y por eso van a analizar una legislación

realizarla y en qué condiciones pero no para hacernos trampas en el solitario eso no lo vamos a hacer nunca eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

presidenta señorías lehendakari en marzo subía a esta tribuna para hacerle una pregunta

ya en los dos primeros meses del año le pregunté qué medidas tenía previsto su gobierno para que la recaudación que empezaba ya a ser negativa en relación con las previsiones

recaudación más acorde con lo que habían sido aquellas previsiones diría que en marzo de este año

y yo creo que en junio de este año recién estrenado junio

aquella alarma encendida se ha convertido en una alarma incendiada porque en estos

en este cuatrimestre las cosas han ido todavía mucho peor eran malas en los dos primeros meses del año son peores en los cuatro primeros meses del año hoy de cada cien euros previstos de crecimiento sobre la recaudación anterior se recauda por debajo es decir hay un decrecimiento

sobre las previsiones que en el mismo periodo se habían hecho en enero y febrero

nuevo que se preveía recaudar se dejaron de recaudar dos tercios pero es que en este caso cuando ha pasado ya marzo y abril nos encontramos con un decrecimiento

la recaudación prevista a la que no se llega quiero recordar que fue diseñada por el consejo vasco de finanzas

por quienes tienen datos por quienes tienen instrumentos por lo tanto se hizo además desde una perspectiva digamos que monocolor sin ninguna influencia de ninguna otra opción política ha habido momentos en los que el consejo vasco de finanzas ha sido plural y ha podido haber más rivalidad

cómo confeccionar los ingresos o determinados objetivos pero en este caso era todo del partido nacionalista vasco es decir que se supone que han actuado

con más unidad de criterio que en otras ocasiones sin embargo a tenor de lo que se previó recaudar y de lo que está pasando

si el consejo vasco de finanzas es un órgano adecuado para

y si realmente hace las previsiones en función de los datos que maneja o si lo hace por algunas consignas que puedan obedecer a otros criterios políticos

de recaudación la diferencia que hay entre lo que se ha previsto recaudar y lo que realmente se está recaudando es una diferencia muy importante muy sensible y por lo tanto hay razones para pensar que algo está fallando y está fallando estrepitosamente supongo

y que aquello que no mejora normalmente empeora y por lo tanto estamos en un momento en el que en nuestra opinión hay que tomar algunas decisiones

no estamos ante un problema de carácter sectorial de carácter puntual sino que estamos ante un problema que afecta al conjunto de la acción de gobierno

políticos económicos y sociales que tiene contraídos este parlamento y su gobierno con la ciudadanía vasca y por lo tanto estamos realmente ante un problema de país y hay que pensar en cuáles son las medidas que se pueden tomar a veces da la impresión de que la recaudación presupuestaria es como un misterio es como algo que

las causas las razones de este comportamiento y yo creo que tenemos que tratar de evitar que esto se convierta en un misterio yo creo que tenemos que tratar

de las haciendas porque efectivamente es un problema de la política y en ese problema que afecta de lleno a todos los compromisos que usted ha contraído y que su gobierno tiene contraído con la ciudadanía

nosotros también estamos concernidos nosotros también hemos tomado compromisos con estos presupuestos

nos sentimos no solamente legitimados para interpelar de esta manera sino que es que además nos sentimos obligados

y para que se puedan tomar algunas medidas en un momento en el que en nuestra opinión empieza a ser ya tarde y en el que las

están llegando de la acción de gobierno no nos gustan demasiado por lo tanto como hoy

debía de ser un problema prioritario de su gobierno nosotros lo que le planteamos es que

que nos diga exactamente qué está pasando y qué piensa hacer para resolver todo esto volvemos a estar en esta tribuna porque hace dos meses

están muy complicadas y entonces usted apeló a que dejáramos pasar el tiempo a que no nos alarmáramos

un trayecto de recaudación que lo hiciéramos más adelante bueno han pasado cuatro meses y

ya no hay alarmas encendidas sino que hay alarmas incendiadas y por lo tanto lo que no podemos es atender a noticias que nos llegan

también de usted también de su consejero de hacienda también de algún diputado general

que son orientaciones más bien hacia la resignación hacia la pereza

tomar decisiones porque el problema de la recaudación hoy no es un problema de que hay que priorizar el gastos hay que actuar con rigor bueno eso hay que hacerlo siempre con el gasto

y lo que no se puede plantear como ha hecho el señor gatzagaetxebarria

para ver si se disuelve esta cámara y ya se convocan las elecciones y no hay este control de la cámara sobre un problema que en el verano con el calor solo no lo va a arreglar pero lo que no es posible

a criterios como el del diputado general de bizkaia que dice que las aceras y las rotondas pueden esperar

no crearan empleo y el empleo no fuera una política social y cuando usted dice

no es cierto porque las del empleo se caen si se cae la inversión esa gran y necesaria política social también se cae por lo tanto yo les veo a ustedes dubitativos

con motivaciones y razones que no tienen ninguna validez política que no constituyen en sí mismo ningún instrumento de acción política y usted sabe que el autogobierno nos da unas herramientas extraordinarias nos da herramientas para recaudar y nos da herramientas para invertir

mucha capacidad en las políticas yo creo que estamos en un momento realmente crítico no sé si de emergencia pero realmente crítico

con setecientos seiscientos millónes menos de recaudación sobre lo que estaba previsto

prácticamente toda la inversión eso es dejar este gobierno en blanco en lo que tienen que ser sus políticas de acción mire yo entiendo algunas cosas que están pasando en euskadi no es posible que en euskadi donde se ha perdido

las tareas suficientes para recuperarla es evidente que los

que pagan menos impuestos los trabajos precarios pagan menos impuestos las inversiones que no se terminan de hacer porque no se dan facilidades a veces a los inversores mueven menos dinero la poca estimulación que hay para el gasto y para que dineros del ahorro que en estos momentos

en los bancos puedan estar en la economía productiva en la inversión tampoco se estimulan en fin hay un montón un sinfín de medidas políticas que cabría hacer por este gobierno y que cabría hacer por este parlamento y que le estoy indicando

con la que se está abordando el problema de la recaudación se pase a la acción política

pero todavía hay tiempo todavía se pueden hacer cosas no se puede confiar todo a si la inversión privada

acumulará dineros y podrá después desarrollar una política de innovación y una política relacionada con determinados grupos de inversión mire a nosotros nos corresponde la economía pública y todo lo que venga de la economía privada y de la colaboración extraordinario

nos corresponde hacer políticas económicas públicas que permitan mediante la inversión mediante el gasto hacer mayor recaudación los recursos mover más la economía y eso exige un plan de choque un plan de choque que ya no está residenciado
en los presupuestos sino en una nueva acción política que yo espero que alguien la explique hoy aquí eskerrik asko prieto jauna denbora agortu da gatxabaetxebarria jauna zurea da hitza erantzuteko

a mí que entendía la labor de oposición que teníamos que hacer

y entiendo la labor de escudero que hace de lehendakari pero me podrá

no puedo discutir con usted porque no le corresponde a usted el resolverlas liderar una política de choque en estos momentos ante la caída de la recaudación

que es quien tiene que establecer las líneas maestras de ese choque de la política

no está pasando es la segunda vez que planteamos esto lo hicimos en marzo lo hacemos ahora no habrá tercera vez porque si la recaudación va así

que no haya quien lo arregle por lo tanto ya no tendrá sentido una tercera vez

y efectivamente lo primero es claridad y quizás usted nos pueda explicar algunas cosas pero no creo que pase de explicarnos algunas cosas

y es por qué por ejemplo hay esa diferencia en la recaudación entre álava

no tiene ningún sentido la diferencia no tiene ningún sentido la explicación que se da

sobre por qué caen algunos de los impuestos entre ellos

sobre sociedades no se explica con claridad qué es lo que está ocurriendo sin embargo mientras tanto lo que está pasando es que la inversión pública está cayendo el gasto público está cayendo se hizo ya el año pasado el año pasado se dejó

millónes de euros en un montón de políticas y este año también se ha dejado de invertir fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico

en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras que anunciaron hace mucho tiempo a bombo y platillo quisieron hacer muchas cosas y que luego no se han hecho

el tren de alta velocidad está absolutamente parado también en la iniciativa que le corresponde al gobierno vasco no solo a la del gobierno de españa

no se sabe dónde está la facultad de medicina y enfermería tampoco sí hay una previsión

no se sabe cómo se podrá componer esa financiación la unidad

se ha frenado en seco sin contar absolutamente nada hoy la financiación de los ayuntamientos y de las diputaciones forales después de haber aprobado una ley municipal está en cuestión porque los recursos no van a llegar

tanto en la previsión de recaudación como en las políticas centrales que se tienen que hacer como también en el volumen del gasto que es la inmensa mayoría de la recaudación lo que gasta este gobierno por lo tanto esta es una política del lehendakari

de alguien que dice oiga qué está pasando aquí pues mire yo le digo lo que está pasando está cayendo la recaudación y lo que está pasando

porque está fallando la política fiscal está fallando la eficiencia de las haciendas para recaudar están fallando los estímulos para poder hacer una política económica

a la inversión pública y ni se está estimulando a la inversión privada mire está fallando que no hay una acción decidida de este gobierno para recuperar la negociación colectiva

y habrá otros impuestos todo esto está pasando y está pasando que el departamento de desarrollo económico está muerto

entre unos y otros pero no está haciendo política de inversión porque le faltan los recurso y porque nadie quiere hacer esos recursos

nosotros no venimos solamente a hacer aquí la crítica porque nosotros no somos un partido pasivo ni somos un partido de testimonio somos un partido de implicación en la gobernabilidad y en el funcionamiento institucional de este país y por eso hemos acordado presupuestos y por eso estamos comprometidos

instituciones pero claro todo esto tiene que tener una correspondencia con quien le corresponde el liderazgo y señor lehendakari es que le corresponde a usted

tiene que salir usted porque usted tiene que decir qué puede corregir en la política económica en la política pública en la recaudación en este país

está perezoso está mirando al cielo y así no se van a arreglar los problemas y bueno pues mire me volverá a contestar con el señor gatzagaetxebarria que le gusta mucho y que la verdad que

trajimos a través de varias iniciativas el asunto del hospital universitario de álava

y a punto de finalizar esta legislatura previsiblemente uno de los últimos plenos de control preguntamos sobre el tema

previstas más la decisión conocida de paralizar la unidad de reproducción asistida prevista con técnicas avanzadas

interpelación la interpelación la dirijo al lehendakari que no sé si tendrá a bien contestar a este grupo y a esta parlamentaria por varias razones

estamos ante una inversión calificada por este gobierno señor lehendakari de estratégica para mejorar la sanidad vasca porque como digo es un asunto tratado de forma recurrente en este parlamento

obviamente no siempre a instancias del grupo popular donde hemos hablado de retrasos incumplimientos donde

por parte de este gobierno y sobre todo teniendo en cuenta que el señor

entendemos que un candidato por álava preocupado de las cuestiones alavesas y por eso consideramos conveniente que sea él el que dé

primero queremos constatar el retraso en el avance de este asunto y menos mal que era considerado una prioridad primero

el anterior plan funcional elaborado por el equipo del partido socialista fue presentado el diecinueve de octubre del dos mil once por el anterior consejero el señor bengoa

y el coordinador del plan funcional del hua señor manzanos

bastaba con hacer alguna revisión de algunos aspectos que podían ser revisables por el transcurso de los meses y viendo que algunas de las necesidades podían

de revisión pero sin cambiar de forma sustancial este plan funcional pero el plan funcional

fue como digo modificado ese plan

funcional hablaba de construir un nuevo hospital universitario en el área de salud de álava

a álava hablaba de la construcción

como digo el hospital de agudos que iba a ser un modelo de referencia en euskadi hablaba de reformar en profundidad el edificio de

bloque técnico para urgencias y radiología un instituto de investigación biosanitaria una unidad docente

edificio de atención ambulatoria entre otras cuestiones pero como digo nuevo gobierno nuevo plan y ese plan fue

tuvimos una versión del plan funcional porque ha tenido múltiples versiones

una comparecencia que criticamos y también por parte de nuestro grupo porque no vino el consejero y eso que era una inversión estratégica y algo prioritario para este gobierno pero en la puesta de largo del nuevo plan funcional de este gobierno el consejero no vino y su viceconsejero y el director de asistencia sanitaria ellos justificaron o este gobierno justificó por el conocimiento de la información

en el proyecto y había que hacer un nuevo plan funcional este plan funcional esta primera versión fue claramente cuestionado por los profesionales de forma interna

que rompía la concepción de atención integral el perjuicio que ocasionaba a los traslados y eso sustanció una comparecencia en el parlamento en donde comparecieron los distintos especialistas y nos decían la acepción

atención integral y lo llevo a que este gobierno se replanteara

hemos planteado numerosas iniciativas para que finalmente llegará el plan funcional al final llegó fue presentado esta vez sí por el consejero

y por los alaveses nos hablaba del edificio de consultas externas

que por cierto se la adjudica este gobierno si ustedes lo inauguraron prácticamente al llegar al gobierno

es una inversión que se ejecutó prácticamente en su integridad a lo largo de la pasada legislatura y me acuerdo muy bien porque a la hora de pactar los presupuestos con el partido socialista

y considerando una inversión prioritaria la mejora de la sanidad en álava aumentar las cantidades inicialmente previstas para la ejecución de esta infraestructura ustedes presentan ese plan funcional

en el parlamento de las inversiones realizadas el ritmo es muy lento señor lehendakari señor consejero ya digo que no sé quien me contestará esperemos que el señor lehendakari siendo el próximo candidato por álava

ustedes poco hicieron culminar finiquitar lo previsto porque ya venía de antes

desalojadas por las consultas externas en planta baja para hospitales de día están en ello pero no se han abierto a día de hoy los hospitales de día

y se ha realizado que está terminado en el pabellón a la cirugía

mucho que realizar todavía y eso que ustedes cuando presentaron

también hubo que requerirles en varias ocasiones para que ya nos remitieran ese plan director y nos explicaron ya la ejecución del proyecto de forma más minuciosa y más al detalle iba por etapas tanto en santiago como en txagorritxu pero vemos que prácticamente no han pasado de la primera etapa

demoliendo el espacio que ha quedado después de trasladar las consultas pero no hay ninguna realidad a día de hoy en el hospital

y en santiago como digo el centro oftalmológico pero no hay tampoco ninguna realidad

con técnicas con las técnicas más avanzadas especialmente la fecundación in vitro se había habilitado ya un espacio

desde luego esta paralización denota y demuestra un nuevo incumplimiento y va a ser claramente una realidad frustrada

se derivan a cruces y estamos hablando de pacientes que tienen que ir tres o cuatro veces en un ciclo es decir en veinte días toda la mañana y desplazarse como digo principalmente a cruces esta era una asignatura pendiente para la población alavesa para disminuir las listas de espera y existe claramente como digo un agravio comparativo palpable con las parejas que residen en álava

y luego el señor lehendakari nos habla de fomentar la natalidad creo que esos anuncios son meros maquillaje para tapar la inacción de este gobierno en políticas de familia porque a la primera de cambio desde luego han paralizado un servicio que tiene mucho que ver con la promoción de la

creo que esto se merece una explicación señor consejero más allá de que se ha pospuesto la ampliación de la cartera de servicios no sé si será por falta de voluntad o por también la caída de la

desde el inicio de la legislatura han sido múltiples las ocasiones en que el departamento de salud

el consejero no el único pero múltiples las que el consejero ha presentado en esta cámara información sobre el conjunto de inversiones

porque entiendo que usted se preocupe por álava como usted sabe

sabe perfectamente que álava no está discriminada y esta cámara es el parlamento vasco es el parlamento de euskadi por lo tanto el desarrollo del conjunto

y también sabe perfectamente que hemos presentado múltiples veces específicamente el plan funcional y el plan director del proyecto provisto para el hospital universitario de álava

rehicimos el plan funcional que dejó prevista el gobierno anterior y lo rehicimos porque entendimos en nuestra legítima responsabilidad de gobierno que estaba sobredimensionado y que no contemplaba

el uso del espacio del hospital de santiago que por cierto lo rehicimos bastante alineadamente con lo que pensaba la ciudadanía

corrieron páginas y páginas de periódicos

cosa que no ha ocurrido esta legislatura por otro lado es legítimo que nosotros reorganicemos en plan una cosa mucho más banal

con una ley por gobierno por lo tanto no me parece un gran pecado arabako unibertsitate ospitalearen plan funtzionala

lortu genuen adostasuna hablamos entonces

de un proyecto en desarrollo que como cualquier otro hospital terciario del tamaño las características y la importancia

con el volumen que tiene con el número de trabajadores con el número de pacientes que atiende funcionando pues tiene su complejidad y es lo mismo en álava que en cualquier otra parte pero en cualquier caso seguimos

a la vía del momento alineando necesidades existenciales y también

posibilidades de financiación los sistemas sanitarios y las políticas sanitarias en el conjunto de las políticas sociales se adaptan a la necesidad social y también se adaptan al momento económico de financiación hablamos de un proyecto pensado en los alaveses y las alavesas de hoy y mañana que ofrece una atención sanitaria de calidad y que progresivamente va reforzando su cartera de servicios para responder a los retos de futuro un modelo

un modelo que en el caso de la osi araba mantiene servicios hospitalarios para pacientes agudos en ambas sedes hospitalarias de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y de acuerdo también en consenso

al tiempo que va concentrando y fusionando y distribuyendo sus servicios buscando la funcionalidad y el aprovechamiento de sus dos sedes hospitalarias santiago y txagorritxu un modelo que está permitiendo una ejecución

y en marcha en función de prioridades existenciales disponibilidad presupuestaria sostenibilidad del sistema sanitario y además de la planificación

para dar respuesta a eventuales necesidades de la actividad asistencial que es la que debe marcar el proceso un hospital señorías que es una realidad realidad que va a seguir creciendo como estaba previsto desde el principio para convertirse en el hospital terciario

quieren y merecen todos ustedes saben que

se ha trabajado de manera continua en este proyecto que siempre hemos considerado estratégico

o si usted quiere fundamental fundamental para álava fundamental para euskadi fundamental para este departamento de salud fundamental para este gobierno dotar a álava de un hospital terciario con visión de futuro un hospital con una cartera de servicios completa

presentado describen una cartera asistencial completa y compuesta por servicios tanto médicos como quirúrgicos que no los voy a enumerar y una dotación tecnológica de primer nivel que es la que tiene si repasa usted el plan funcional

señáleme en qué hoja encuentra usted que este consejero o este gobierno

en esta legislatura de la unidad de fertilidad ni en los presupuestos de este año

ni en el plan director para esta legislatura pero bien

comprobará que en los últimos cuatro años se han invertido en álava más de veintiuno millónes de euros veintiuno millónes de euros en la finalización de las obras y en el equipamiento

de salburua y zabalgana veintiuno millónes de euros

donde con el presupuesto del año dos mil trece además de pagar el finiquito de la obra se pagó la dotación de cardiografía ecografía robótica de laboratorio

otra tecnología equipamientos de radiología digital una sala blanca de alergología etcétera

la remodelación del área de cirugía mayor ambulatoria el policlínico y las consultas de oftalmología y la nueva área de rehabilitación en la sede de santiago

un escáner nuevo para el hospital de santiago el traslado y acondicionamiento de los hospitales de día

tal y como nos comprometimos del nuevo edificio de ampliación de urgencias cuidados intensivos

salas de dilatación y paritorios realidades

los proyectos que iniciarán este año de nuevos centros de salud de campezo y amurrio yo no sé señora garrido si la cartera de servicios actual y la prevista y estas cifras de inversión

con la realidad actual como no considerar prioritaria la ejecución del proyecto del hospital universitario de araba pero permítame que yo

va a ser el candidato de su partido por álava pero quizás viendo la evidencia de su actuación

no salir a esta tribuna eso sí próximamente seguro que asistimos todos los alaveses

millónes pero como vemos esas promesas quedan en saco roto viendo lo que ha hecho este ejecutivo en relación a la sanidad en álava hablamos de realidades sí efectivamente señor consejero realidades edificio de consultas externas inaugurado en octubre de dos mil trece

hoy después de cuatro años del gobierno del partido nacionalista vasco

que no venía a inaugurar obras no la verdad es que las pocas obras que ha inaugurado son herencia claro el centro de consultas externas y los dos centros de salud a los que ha hecho referencia zabalgana

hombre quiero recordarle que los presupuestos del dos mil trece tuvieron que ser prorrogados porque ustedes no tuvieron los apoyos necesarios para sacar los primeros presupuestos adelante por lo tanto

de este ejecutivo vinieron más tarde qué me dice

que está pendiente de construcción y que era absolutamente prioritario para seguir ejecutando las inversiones

qué me dice de la rehabilitación en santiago absolutamente pendiente mira me habla de los crónicos ustedes han querido dar otra solución a los crónicos pero sabe cuál es la realidad señor consejero que después de cuatro años de gobierno del partido nacionalista en álava

se tienen que seguir desplazando a leza porque no tienen una infraestructura específica o no están solucionadas

en vitoria cuando vitoria representa el ochenta por ciento

la población en el conjunto de álava qué ha pasado con la unidad de reproducción asistida con esas técnicas avanzadas que estaban previstas hombre ahora me dice que no estaban en la cartera de servicios

reconocen que rebajaron sustancialmente la cartera de servicios previstos en el anterior plan funcional

no la recogieron en el nuevo plan funcional está claro que su plan funcional era menos

pero cuáles son las razones de paralizar una inversión prevista con espacios habilitados ya con profesionales implicados en el proyecto señor consejero y con ya compras de materiales concretos

son las razones falta de voluntad que cuando hay que ajustar lo primero que toca en este caso es a la sanidad alavesa falta dinero

no quitar el dinero de lo que constituye una prioridad por lo tanto está claro

con los gobiernos nacionalistas no avanza la sanidad en álava la pasada legislatura nosotros

prioritario avanzar en inversiones en el territorio alavés para igualarnos a la situación de bizkaia y gipuzkoa conseguimos avanzar algo

funcional un nuevo gobierno un nuevo cambio y ustedes además después de darnos a conocer sus nuevos planes claro tiene que haber nuevos planes encima no los cumplen

los profesionales y por todos los que vivimos en esta ciudad es que lo vemos

o sea que está claro que la sanidad en álava no es una prioridad para este gobierno y que a las primeras de cambio cuando hay que ajustar le toca a la sanidad en álava y en este caso a la mejora de la unidad de reproducción asistida con las técnicas más

señor lehendakari se lo pregunto a usted dónde ha quedado su apuesta y su compromiso personal

en este territorio porque desde luego en lo que llevamos estos cuatro años de gobierno
no lo vemos no sé si en los próximos meses nos hará muchas promesas eskerrik asko garrido andrea darpón jauna zurea da hitza

que me escuchara yo entiendo que a usted más que importarle la sanidad alavesa hoy ha venido usted a interpelar al lehendakari como candidato a álava probablemente el mejor candidato

estábamos hablando de la sanidad alavesa y por lo tanto va a permitir usted que

lleva estos temas sí para el lehendakari sí para el gobierno

y mejorando día a día no se preocupe usted así lo entendieron los ciudadanos alaveses en las últimas elecciones autonómicas y ya veremos el resultado en las siguientes porque al final lo que prima no es su opinión ni la mía

va a ser la del conjunto de los ciudadanos alaveses y alavesas esos que están atendidos todos los días

y están los que son de álava en el hospital de santiago están en el hospital de txagorritxu están en los centros concertados

dispersos por los servicios los tendremos agrupados en una única unidad pero están atendidos no hemos tenido a lo largo de la legislatura ninguna queja diciendo soy un crónico

pero bueno no se preocupe mire la sanidad alavesa

el grupo parlamentario este partido nacionalista vasco veinticinco años de treinta y tres de osakidetza

y los otros ocho afortunadamente el partido socialista vamos a ver qué les pasa a los alaveses si les toca a ustedes un día es un proyecto absolutamente prioritario para este consejero para el departamento de salud y para el gobierno vasco desde el primer minuto de la legislatura porque para nosotros

son importantes en el trabajo del día a día a eso nos dedicamos hace usted una interpretación francamente interesada cuando afirma que se han paralizado inversiones la realidad como usted conoce es que se le trata a álava como al resto de los territorios históricos se priorizan unas inversiones sobre otras

las oportunas y necesarias y otras simplemente se posponen ha sido así siempre y con ese criterio es donde se enmarca la decisión de no ampliar

asistida del hospital universitario de álava que no quiere decir que más adelante no se vaya a reconsiderar el proyecto que por cierto no le habrá oído usted a este consejero decir que va a ampliar la cartera de servicios de la unidad de reproducción humana de álava

alaveses y alavesas estén desatendidos ya que es un servicio

por lo que no hay ninguna paciente o pareja desatendida

encarnizarme no conozco ninguna parte del mundo donde el problema de la natalidad en la sociedad

que igual el consejero de políticas sociales y empleo pues le consulta porque yo no sabría ayudarle con los servicios de ginecología obstetricia a mejorar la natalidad en euskadi actualmente en el sistema público de euskadi

en cuatro hospitales de la red uno en araba dos en bizkaia

el conjunto de las técnicas en función de la complejidad

las técnicas más habituales y de mayor demanda se hacen en los cuatro y las más complejas como la fertilización in vitro esas se ofertan en el hospital universitario de cruces

en el caso de las parejas de álava después del estudio inicial de esterilidad que se hace aquí

se deriva a cualquiera de los otros dos centros en función del criterio de la pareja o del ginecólogo o ginecóloga

durante el año dos mil quince el año pasado se han tratado en álava aquí en álava

con seiscientos catorce ciclos y se han derivado ciento noventa y siete

el cincuenta y ocho por ciento de las parejas que demandan técnicas de reproducción se atienden en álava además puede estar usted muy tranquila si necesita la actual unidad de ginecología y reproducción del hospital universitario

todos y cada uno de los servicios que se presta actualmente

una enfermera y una auxiliar de enfermería y es cierto

sí gracias presidenta lehendakari señores consejeros uno de los más graves problemas que tiene españa es la politización de la justicia españa tiene muchos problemas pero desde luego este es

uno de los principales la justicia en españa está politizada están politizados el consejo general del poder judicial el tribunal supremo y el tribunal constitucional es urgente por lo tanto despolitizarla

y profesionalizarla es decir obligar a los principales partidos políticos a sacar sus manos

de modo que dejen de condicionar la justicia en españa el partido nacionalista vasco ha participado también del reparto de la justicia y por lo tanto de su politización como lo han hecho el partido popular y el partido socialista obrero español durante

es urgente por lo tanto llevar a cabo esa reforma como otras muchas hoy ya indispensables y urgentes las principales instituciones del estado están tomadas por los partidos políticos españoles tras un proceso de privatización de todas esas instituciones que han

sea de baja calidad están tomados por los partidos políticos el consejo general del poder judicial el tribunal supremo y el tribunal constitucional también la fiscalía pero también los órganos reguladores el banco de españa la comisión nacional del mercado de valores

los tribunales de cuentas o las radios y televisiones públicas todas o las principales instituciones del estado están tomadas por los principales partidos políticos eso que se llama o se llamaba en su momento la privatización de estas instituciones en favor

de los principales partidos políticos esta politización digamos que de todo esta pretensión de los partidos políticos de controlarlo todo

lo ha contaminado todo y hace que muchas cosas funcionen muy mal en españa y como decía antes que la calidad de la democracia sea menos

todo esto hay que reformarlo para regenerar la política en españa y por tanto también en euskadi dado que ese estado de cosas nos afecta también a los ciudadanos vascos y por esto yo pregunto también evidentemente sobre esta cuestión y sobre estas cuestiones

y al gobierno vasco hace falta voluntad política para reformar y regenerar todas esas instituciones y llevar a cabo las reformas que españa necesita hoy mismo leemos podemos leer en un medio de comunicación que los jueces cifran en dos mil los investigados por corrupción política y exigen más medios diez son los jueces por cada cien mil habitantes en españa

de media europea españa por lo tanto tiene un problema evidente de falta pero creo que el problema fundamental que tiene españa es que no hay independencia judicial y la independencia judicial y la profesionalización de la justicia

para luchar también contra esa lacra que es la corrupción política son decenas y decenas de casos que afectan a la práctica totalidad

decenas y decenas de casos de corrupción upyd se ha mantenido a salvo de toda esa basura de corrupción de todo ese barro de corrupción nos hemos mantenido limpios desde dos mil siete cero imputados y cero corruptos

compromiso diáfano contra la corrupción política y múltiples iniciativas parlamentarias para luchar contra el amiguismo la opacidad

la mala gestión el derroche y la corrupción política incluidas también actuaciones ante la justicia caso bankia caso de las preferentes

compromiso de upyd en contra de la corrupción política es algo que la práctica totalidad de los partidos políticos hoy día la reconocen aunque no sea públicamente upyd se negó a formar parte de los consejos de administración de las cajas de ahorros denunció su politización también y se negó a estar en los consejos de administración de las diferentes televisiones públicas nos negamos a participar de la tarta

hemos defendido múltiples iniciativas para profesionalizar la justicia suprimir los aforamientos despolitizar las principales instituciones del estado y en general perfeccionar y regenerar la democracia con hechos no con palabras no con humo no con pura cosmética que es lo que ahora mismo se lleva en españa con hechos

con actuaciones concretas con compromiso el actual sistema de elección de los miembros del consejo general del poder judicial se ha demostrado como un completo fracaso

no es realmente imputable el mecanismo legal en sí mismo considerado sino sobre todo a la incapacidad de los partidos políticos españoles para dejar el poder judicial

y de sus intereses particulares el consejo general del poder judicial ha sido un campo de batalla partidista tanto en la elección de sus vocales como en su funcionamiento

e influencia tiene muchas tareas que desarrollar informe de leyes en cuestiones de política judicial facultad de proponer reformas legislativas participación en el trámite de nombramiento del fiscal general del estado y de los magistrados del tribunal constitucional

y por encima de todo el control de los ascensos en la carrera judicial a determinados puestos es decir decide quién sube y quién no la politización de una institución con tanto poder ha significado la politización de todo el sistema judicial lo que es profundamente antidemocrático y muy negativo para la sociedad en su conjunto por esto

por eso han estado ahí en el consejo general del poder judicial para condicionarlo todo y para impedir que la justicia sea realmente independiente en españa

y tribunales superiores son algo perfectamente conocido y comentado públicamente y al vocal que se sale de esos bloques se le llega nada menos que a calificar

politización ha provocado un deterioro muy grave del sistema judicial

que una fundación internacional sin ánimo de lucro situaba recientemente a españa en el puesto sesenta de ciento treinta y tres en cuanto a independencia judicial por detrás de países con namibia

estamos en esa situación estamos realmente impulsar las reformas que españa necesita no sería tan complicado son

entre los principales partidos políticos y con el mayor consenso es cuestión de voluntad política no es muy difícil no debería ser muy difícil hacerlo el problema hasta ahora

voluntad política para llevar a cabo esas reformas por qué fundamentalmente porque los partidos políticos principales se han terminado convirtiendo en organismos cuya función principal o primordial ha sido y es defender sus propios intereses particulares y partidarios

acaban funcionando de esa forma y en lugar de anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses de los partidos políticos hacen justo lo contrario

nuevos lo hemos comprobado se han terminado comportando de forma parecida a los viejos es mentira esto de que haya que sustituir la vieja política por la nueva política sin más realmente lo que hay que sustituir es la mala política por la buena política y la buena política consiste en llevar a cabo todas estas reformas

no han querido llevar a cabo pudiéndolo hacer una justicia eficaz moderna con medios para investigar todo lo investigable y con independencia

que nuestra democracia necesita imperiosamente y que la sociedad civil debe exigir enérgica e incansable cada cuatro años es decir cada vez que se convocan elecciones los principales partidos políticos introducen en sus programas electorales algunas de estas reformas y también concretas reformas para profesionalizar la justicia

esto es lo que nosotros humildemente pretendemos ayudar a cambiar a través de esta interpelación dirigida al gobierno vasco evidentemente este no es un asunto que pertenezca únicamente

exclusivamente del gobierno vasco o del propio lehendakari pero creo que desde aquí también podemos ayudar o deberíamos ayudar a que esas reformas pudieran llevarse a cabo por eso interpelamos

por el conjunto de medidas que piensa tomar o ayudar a tomar para despolitizar la justicia en el conjunto de españa gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

tomando la reflexión que ha formulado usted al término de la suya porque efectivamente su interpelación de hoy sobre las medidas que

yo creo que guarda una similitud no desdeñable con otra interpelación que

hace quince días en la última sesión de control a propósito de una cuestión semejante la similitud no se producía

aunque ambas se refieren a cuestiones relacionadas con la administración de justicia sino con el hecho de que afectan a cuestiones de interés general

con mucho del campo de actuación del gobierno vasco y del ámbito competencial en el que desarrolla su actividad pero con mucho

que tiene usted una cierta tendencia a plantear iniciativas a pedir cuentas y razones al gobierno vasco en relación con materias

cuya competencia usted no ha reivindicado jamás porque yo francamente y corríjame si me equivoco no recuerdo haberle visto a usted nunca exigiendo una mayor dotación de competencias a la comunidad autónoma vasca en materia de justicia no le recuerdo jamás

no sé si además también aquí preconiza usted la devolución de competencias al estado a lo mejor sí no sé pero sí puedo constatar

no reivindica la competencia y sin embargo en relación con la competencia

que este no se las puede dar porque son materias y asuntos que todavía están residenciados en otros ámbitos institucionales en cualquier caso es cierto efectivamente que la comunidad autónoma la de euskadi se sitúa entre las que los

las competentes en materia de justicia es una expresión generosa en lo que se refiere al ámbito

competencias autonómicas en materia de justicia en realidad se circunscriben a lo que se recogió originariamente

muy pronto ya en la década de los ochenta el tribunal constitucional se encargó de desnaturalizar completamente unas competencias que básicamente se circunscriben no ya a la justicia ni tan siquiera a la administración de justicia sino

definió como la administración de la administración de justicia y más concretamente se concreta en la provisión de medios materiales y humanos no judiciales

que sea la idea que se pueda tener sobre lo que es la politización de la justicia usted ha hecho una explicación una exposición larga sobre lo que entiende que es

por parte de los partidos políticos de muchas instituciones no solamente del ámbito de la justicia pero cualquiera que se tenga la idea de lo que es la politización de la justicia es cierto o es evidente que no se manifiesta ni a través de los medios materiales que el gobierno vasco pone a su disposición no se manifiesta ni a través de las sedes judiciales ni de los edificios

no judicial al servicio de la administración de justicia por tanto los elementos los instrumentos que gestiona el gobierno vasco en relación con la administración de la administración de justicia son precisamente

de los que ha hecho usteden su repaso o sea que usted

que se manifiesta precisamente en aquello que no le ha sido transferido porque yo quiero suponer que si la justicia está politizada esa politización según usted se manifiesta fundamentalmente a través de la actuación de los jueces y tribunales

con cuya trayectoria profesional el gobierno vasco prácticamente no tiene nada que ver

en euskadi sino que le pregunta sobre lo que va a hacer en el conjunto de españa fíjese mucho más allá de nuestras fronteras personalmente

maneiro pienso que la cuestión que usted plantea es una cuestión compleja muy amplia

y con un amplio nivel de consenso más amplio posible usted ha puesto algunas de las claves de lo que entiende que es la base o el quid de la politización de la justicia y yo creo que ha puesto claramente de manifiesto que efectivamente los consensos que es necesario concitar

los acuerdos que es preciso alcanzar las conversaciones que es preciso entablar para alcanzar ese objetivo que usted marca como deseable

una interpelación planteada en una cámara autonómica que prácticamente no tiene ninguna competencia en estas materias yo creo que aquí básicamente

compartido posible sobre la situación actual y en segundo lugar el diseño digamos de una estrategia que arranque del

y del rigor digo esto porque en primer lugar por lo que se refiere al diagnóstico compartido francamente no creo que la mejor vía el cauce más idónea sea precisamente el de plantear una interpelación al término de una legislatura

en fin esto le puede dar efectivamente para generar algún titular en algún medio de comunicación que ponga de manifiesto que usted candidato de su formación política a las cortes generales pues se preocupa por estos temas muy bien no pero desde el punto de vista operativo y realmente eficaz pues francamente

para un brindis al sol elegante con un pronunciamiento declarativo muy estridente de la cámara en un sentido u otro pero desde el punto de este afectivo poco más por lo que se refiere a la segunda cuestión al discernimiento y al rigor con el que hay que abordar esta cuestión

hace referencia a realidades muy diferentes y no todas ellas son susceptibles de tratamiento homogéneo no todas pueden ser abordadas de la misma manera no es lo mismo la politización de un tribunal

del poder judicial que es la expresión que utiliza la constitución para referirse al consejo general del poder judicial

órganos politizados el tribunal constitucional el tribunal constitucional no forma parte propiamente del poder judicial

que ejerce competencias muy importantes yo comparto con usted la idea de que el tribunal constitucional está politizado pero esto está tan asumido que

autores que tratan esta cuestión desde el punto de vista del derecho público admitan esto yo

político es un tribunal político lo que pasa es que tiene que expresarse a través de argumentos jurídicos pero su única limitación es esa por lo que se refiere a su nombramiento usted ha hecho referencia a él como la razón determinante que

los doce miembros del tribunal constitucional los designan cuatro el congreso de los diputados cuatro el senado dos el gobierno central y dos el consejo general del poder judicial

no solamente politizado y además rabiosamente centralizado porque ese órgano resuelve de los conflictos de competencias entre el estado y las comunidades autónomas

órganos instituciones ubicadas en el aparato central del estado ninguno de ellos es nombrado ni directa ni indirectamente por las comunidades autónomas por tanto politizado y centralizado una cuestión muy diferente es la composición del órgano del gobierno del poder judicial donde tiene sentido

una presencia puesto que estamos hablando de una función de gobierno

pero que no tiene porque excluir a los representantes de los ciudadanos en la gestión

general de politización de la justicia que son esencialmente distintos

y francamente yo creo que en el contexto de esta interpelación y en una cámara insisto con una competencia francamente limitada para abordar este tema pues estamos atados de manos

no se excede con mucho eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

sí gracias señor consejero me ha dicho básicamente lo que yo suponía que usted me iba a decir porque en fin poco a poco nos vamos conociendo y

usted sino en general todos los gobiernos tratan de decir este no es un asunto que a mí me corresponda y por lo tanto

algunas cosas que no dependen tanto de nosotros pero que realmente nos afectan a nosotros como ciudadanos vascos si hay algo que nos afecta a nosotros como ciudadanos vascos es lógico pensar que un representante de los ciudadanos vascos pregunte al gobierno vasco es decir a su gobierno qué medidas piensa tomar o qué actuaciones

eso y de esa forma los ciudadanos vascos seamos mejor tratados y en este caso concreto podamos recibir una mejor justicia una justicia independiente y entre otras cuestiones seamos capaces de luchar más y mejor contra esa lacra de la corrupción política que también nos afecta como ciudadanos vascos por lo tanto mi obligación es preguntar al gobierno vasco porque en este caso concreto tiene alguna cosa que decir no es que dependa este asunto

ni mucho menos pero creo que el gobierno vasco algo podría hacer para cambiar las cosas en este sentido y para que la justicia en españa siga estando politizada teniendo en cuenta además que es el partido nacionalista vasco quien gobierna euskadi y que el partido nacionalista vasco ha participado de esa politización de la justica y que lo ha hecho voluntariamente es lógico

por qué piensa hacer el gobierno vasco en relación a esta cuestión este es un asunto muy importante en este parlamento debatimos prácticamente de todo debatimos de cosas que ocurren a miles de kilómetros y que no nos afectan en absoluto en diferentes comisiones etcétera asuntos interesantes asuntos pintorescos en algunas ocasiones pero que no nos afectan para nada y ciertamente dedicamos bastante tiempo

cómo no vamos a hablar en todo un parlamento vasco con la importancia que tiene de la politización de la justicia cómo no vamos a instar al gobierno vasco a que trate de tomar medidas o hacerlas llegar al gobierno de españa y al conjunto de los partidos políticos para que saquen

de la justicia para poder tener una justicia que pueda ser considerada profesional y que funcione de manera independiente esta es una de las interpelaciones más importantes que se han realizado

nada más y nada menos estamos hablando de la justicia en españa de la independencia de la justicia formamos parte de españa por lo tanto este es un asunto que nos importa mucho

el ámbito de la comunidad autónoma sin embargo aparte de todo lo que ya le he dicho y le recuerdo también que el lehendakari es el representante ordinario del estado en nuestra comunidad autónoma

algo también tendrá que decir porque ya digo esa colonización esa politización de la justicia nos afecta a nosotros como ciudadanos vascos quién es el gobierno vasco ustedes por lo tanto es normal que yo como representante de los ciudadanos

en relación a que son asuntos que trascienden con mucho el ámbito de la comunidad autónoma lo dudo dijo cosa parecida en relación a los aforamientos vino a decir que

sabemos que la supresión de algunos de los aforamientos existentes es competencia de la comunidad autónoma del país vasco por lo tanto con voluntad política siempre hay cosas que se pueden hacer otra cosa es que usted me diga este es un asunto incómodo años hemos formado parte de la tarta de la justicia y en fin es mejor no hablar del tema pero este es un asunto muy importante cómo no va a poder hacer nada el gobierno vasco

y todos los demás partidos políticos por lo tanto este es un asunto que nos incumbe en todo caso señor consejero usted es una persona

sobre la cuestión por la que le pregunto no hay ningún tipo de duda usted considera que en españa la justicia está politizada sí o no qué reformas llevaría usted a cabo para profesionalizar la justicia en fin yo creo que ahora mismo hay un consenso general

está politizada colonizada por los partidos políticos usted seguro que tiene una opinión tiene que decir algo más de lo que usted ha dicho tiene que mojarse es un representante importante
tiene que hacer todo lo posible para cambiar esta situación es lo que le pido eskerrik asko maneiro jauna

yo le reconozco a usted también una capacidad política innegable una inteligencia que no pongo en cuestión creo que nadie la pone en esta cámara pero no me

sabía que usted no iba a hacer aquí un planteamiento radical de exigencia de reivindicación de todas las competencias en materia de justicia para euskadi no lo iba a hacer no porque eso hubiese sido coherente con su planteamiento si usted dijera

que se pueda crear un poder judicial propio y a partir de ahí voy a exigir que no se politice el poder judicial propio de euskadi pero no entra usted ahí usted quiere

recabar la opinión del gobierno o de otros grupos parlamentarios en relación con un asunto que no corresponde decidir a este gobierno ni tampoco a esta cámara porque

de nuestras competencias yo no le afeo no sé si ha dado esa impresión pero no le afeo la presentación de una iniciativa como esta interpelación en absoluto

perfectamente usted ha hecho referencia a ello en su primera intervención va a ser candidato de una formación política encabezando la lista de madrid al congreso de los diputados y tiene que aparecer preocupado por las cuestiones de estado

va marcando un perfil me parece lógico y perfectamente comprensible yo no le afeo todo lo contrario lo comprendo perfectamente

en la última interpelación usted decía que yo había afirmado que el gobierno vasco no tiene nada que

lo que dije es que el gobierno vasco puede hacer en relación con los aforamientos

lo mismo que puede hacer usted y que usted se dedica a requerir a estos y a aquellos a instar a estos y a aquellos para que hagan lo que usted puede hacer presentar una iniciativa aquí en esta cámara para que

y de los de los miembros del gobierno si esto no hace falta que lo haga el gobierno lo puede hacer usted sin más eso es lo que le requería o lo que le comentaba lo que le hacía notar en la pasada interpelación

que le dije que me daba la impresión de que usted ejercía más como cronista que como parlamentario porque lo que le gusta es recabar las opiniones de los demás de los grupos parlamentarios del gobierno pero luego no presenta las iniciativas que tiene que presentar realmente

antes en su primera intervención ha dicho usted que para eliminar la politización de la justicia bastarían y sobrarían cinco seis o siete medidas

con cinco seis o siete medidas sería suficiente para despolitizar la justicia en el estado español bien

en consonancia con lo que le sugerí en la última interpelación que planteó a propósito de los aforamientos por qué no las presenta ahora en la cámara por qué no las registra regístrelas esas medidas regístrelas

próximamente cuando sea diputado en la cámara baja porque a lo mejor no alcanza ese honor

es que usted pide al gobierno pide a las cortes generales que adopten medidas que usted puede adoptar por eso pongo en cuestión su compromiso real es verdad que usted insiste sobre estos temas vuelve sobre ellos hace declaraciones expresasu preocupación es verdad

las facultades que usted tiene como parlamentario usted no es un ciudadano cualquiera de la calle es un parlamentario

un escaño además con el privilegio o con la ventaja con respecto a otros que él solo conforma un grupo parlamentario

por veintisiete diputados todas las tiene usted solo concentra usted en una sola persona en un solo escaño todas las facultades que otros grupos parlamentarios

por qué no activa las facultades que le reconoce el reglamento para tomar efectivas estas medidas

en absoluto la he negado seguramente su apreciación y la mía su diagnóstico y el mío serían distintos

sobre el consejo general del poder judicial no tenemos planteamientos coincidentes pero puesto que usted

para acabar con la politización preséntelas regístrelas en la cámara

rojo andrea zurea da hitza sí gracias presidenta y buenos días

respecto al tema de la juventud llevamos unas semanas en las que hemos debatido

en este pleno a diferentes iniciativas de diferentes grupos parlamentarios estas iniciativas nacen de unas

uno fue una comida con la patronal cebek y otra respecto a un encuentro que usted tuvo con las juventudes de su partido

hizo unas declaraciones absolutamente contrarias a las que planteó a la patronal de cebek por un lado hablaba de la necesidad incluso la invitación a los jóvenes a salir fuera de euskadi para poder internacionalizar su formación

a los jóvenes vascos efectivamente el paro es uno de los mayores problemas que tiene euskadi igual que españa

soluciones concretas la política de juventud en este gobierno no ha existido

lo que preocupa a los jóvenes intentando plantear propuestas concretas

por tanto una vez escuchadas esas intervenciones contradictorias

y las otras intervenciones con las juventudes de su partido teniendo en cuenta

cómo cree usted que deben proceder los jóvenes para poder acceder en condiciones dignas al marco laboral en euskadi marchándose fuera esperando que aparte de

abran sus puertas es qué acaso usted no pretende hacer nada eskerrik asko rojo andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

todos mis pronunciamientos desde el inicio de la legislatura en relación al empleo y al empleo juvenil han tenido una misma línea impulsar una política económica que genere oportunidades de empleo para la juventud en euskadi y le diré también que los datos de paro registrado en el mes de mayo indica un descenso interanual del desempleo del ocho coma tres por ciento

de las cuales personas menores de veinticinco años ese segmento de menores de veinticinco años supone

le diré también que los primeros cinco meses del año se han registrado en euskadi trescientos cincuenta y dos mil ciento noventa y cuatro contratos

es decir un nueve coma siete por ciento más de los cuales

de menores de veinticinco años se ha producido un incremento en contratos del diecinueve coma dos por ciento yo no me voy a enredar en la cuestión de lo que dije en el encuentro con los jóvenes del partido nacionalista vasco porque sobre eso

planteada por la señora zulaika aquí en esta misma cámara y sobre las que también me he pronunciado en relación a lo que son mis pronunciamientos de manera lineal en relación a esta cuestión y no me voy a enredar porque además también pretendió usted

en un pleno por lo tanto ya se ha debatido sobre esta cuestión y lo que yo he dicho linealmente durante toda la legislatura linealmente sobre el empleo y el empleo juvenil está

están pactadas con el partido socialista plan de empleo juvenil de enero dos mil catorce y vigente hasta el año dos mil dieciséis

lehen aukera prácticas en empresas vascas en el extranjero plan talento joven formación de personas desempleadas sistema de emprendimiento apoyo al autoempleo pregunta usted cómo debe proceder la juventud pues mire además de lo que he dicho durante toda la legislatura subscribo el acuerdo para la declaración de la década de empleo juvenil por la organización de naciones unidad impulsada también desde este gobierno vasco

fortalecer sus capacidades aprovechar las oportunidades de acceso al mercado laboral para contar con experiencia de trabajo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias presidenta mire señor lehendakari la intervención de esta parlamentaria no pretende fastidiarle a usted ni molestarle si sus declaraciones son lineales o no lineal es el tono las declaraciones en fin usted no es una persona cualquiera que opina en un foro y dice en un lugar váyanse fuera

efectivamente ustedes han pactado con el partido socialista lo que ha dicho

si el partido socialista no mete determinadas cosas en los acuerdos que hacen con el partido nacionalista vasco ustedes no harían nada y lo que le digo es

y efectivamente eso va para mejorar la situación en este caso del empleo en los jóvenes pero lo que está claro es que no ha solucionado usted nada que ha mejorado los niveles de paro sí no solo gracias al pnv sí han mejorado

no se trata de que haya menos personas apuntadas en lanbide

de qué tipo de contratos se hacen de cuántos empleos temporales hay

y de la verdadera oportunidad que tienen los jóvenes para llegar al empleo estamos hablando de eso no se trata de echarle a usted la responsabilidad de que ustedes no han hecho nada

de algo sirve cuando algunas cosas se están haciendo pero usted sabe que hoy hay una demanda por parte de la juventud vasca de falta de oportunidades y de falta de condiciones dignas de empleo y eso es algo que a este grupo parlamentario le preocupa y por eso se lo plantea y usted cuando se les implica en algunas políticas concretas siempre se lo toman en plano

esto lo tenemos pactado con el partido socialista de euskadi siempre es lo único que usted sabe decir como argumento para intentar contrarrestar la opinión

lo que está claro es que los jóvenes no tienen oportunidades lo que está claro es que usted dice que se marchen fuera y al mismo tiempo dicen a las empresas que abran sus puertas
lo que usted nos debería decir es qué va a hacer usted y no lo dice eskerrik asko rojo anderea lehendakari jauna zurea da hitza

no se preocupe usted mire es público y notorio que en cada ocasión ha solicitado al mundo de la empresa la integración laboral de la juventud y empleo de calidad en todas las ocasiones

es conocido que he explicado esta cuestión aquí hace quince días he remitido también una carta a la presidenta del consejo de la juventud quien me ha respondido de forma positiva agradeciendo las explicaciones y remitimos sus aportaciones he estado reunido

expectativas falsas a la juventud solo reitero que desde hace veintinueve meses euskadi crece y el empleo también solo reitero que las empresas vascas necesitan contratar

y estas empresas han dado a conocer el perfil de conocimientos capacidades y actitudes que demandan para incorporar a la juventud a estos empleos yo no entiendo que critique usted

por eso aprovecho para reafirmar nuestro compromiso con el empleo juvenil el año pasado ese compromiso se materializó en mejorar la empleabilidad

sí gracias señor lehendakari le pregunto por el desplome de la recaudación fiscal en euskadi por qué se ha producido este desplome de la recaudación fiscal qué consecuencias va a tener y qué medidas va a tomar

el gobierno vasco sobre todo para salvaguardar los intereses de los ciudadanos y en concreto el estado del bienestar todo lo que tiene que ver con la educación la sanidad

lo cierto es que se ha producido un desplome de la recaudación fiscal en este primer cuatrimestre y esto es de una enorme gravedad la recaudación de impuestos tiene signo negativo aunque los ingresos de gipuzkoa han crecido el ocho coma dos por ciento

las estimaciones presupuestarias de ingresos que se establecieron en un aumento del siete por ciento por lo que tanto las diputaciones como el gobierno deberán tomar medidas para cuadrar las cuentas más allá de las erróneas estimaciones realizadas en su momento y

es momento de que en este caso el propio gobierno el lehendakari explique en sede parlamentaria las medidas que va a tomar para cuadrar los presupuestos y cuáles van a ser

planteamos desde upyd que se mantengan al margen de cualquier tipo de recorte aquellas partidas que implican servicios públicos atención a las personas más vulnerables gasto

lo que ni este gobierno vasco ni otros gobiernos cuyas decisiones nos afectan han hecho en el pasado el gobierno este y el otro suelen recortar

pero luego recortan aunque luego hablen de ajustes esto es lo que habitualmente suele hacerse sobre todo en este caso concreto cuando las previsiones de ingresos no se cumplen y por lo tanto de algún lado habrá que recortar tendrán ustedes que recortar nosotros planteamos que no se recorte nada de lo que tenga que ver con el estado del bienestar

con todo eso que es tan importante para tantos ciudadanos vascos queremos saber por lo tanto qué es lo que va hacer el gobierno no queremos que nos diga que hay que esperar

para ver qué ocurre a partir del día veintiséis de junio fecha precisamente de las elecciones generales sino

por qué se hicieron esas previsiones y no se han cumplido por qué se ha desplomado la recaudación fiscal y cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno vasco gracias

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor maneiro las explicaciones sobre las circunstancias ya las ha dado también el consejero de hacienda y finanzas el señor gatzagaetxebarria en una interpelación anterior en la sesión de hoy

se encuentran con datos negativos y un tercero con datos positivos y la posición del gobierno sí es de prudencia y desde luego

del déficit en el estado en el primer cuatrimestre confirman que euskadi

y yo le recuerdo también el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno vasco para consolidar esa previsión de flexibilización de los márgenes del déficit antes de que finalice el año

del veintiséis de junio y no es cierto porque la decisión del gobierno está tomada rigor sí y prudencia y es porque la cuestión es que el irpf se liquida a finales de junio

del veintiséis de junio próximo señor maneiro la decisión adoptada por el gobierno es firme no vamos a recortar los pilares del modelo vasco de protección social sanidad educación y lucha contra la exclusión

la calidad en los servicios públicos esenciales para la ciudadanía no lo hemos hecho antes ni lo haremos después de las elecciones recortes en lo que son los pilares del modelo vasco de protección social el ejemplo lo tiene además usted en el ejercicio

tuvimos también que prorrogar los presupuestos del año dos mil doce y mantuvimos los pilares del modelo vasco de protección social y lo tiene también como ejemplo

reforzar el impulso de la economía para la creación de empleo porque esta es

yo lo que recuerdo son recortes recortes presupuestarios y también recortes producidos a través de inejecuciones presupuestarias esto es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos

porque usted decía recientemente en un medio de comunicación el bajón recaudatorio obligará a invertir con rigor en lo importante yo pensaba que esto ya se hacía

efectivamente eso le pedimos que no haga más recortes pero dónde va a recortar entonces

en las inversiones productivas dónde sobraba algo había partidas presupuestarias que estaban infladas

de ahí se va a recortar eso es lo que tiene que aclarar porque si hay un bajón presupuestario como consecuencia

pues evidentemente alguna decisión habrá que tomar lo que no puede decir es que no va a haber ningún tipo de ajuste y se va a invertir con rigor como hasta ahora no algo habrá que hacer qué van a hacer

del mantenimiento de los pilares del modelo de protección social y del estado de bienestar en euskadi incluso con presupuestos prorrogados en el año dos mil doce para el año dos mil trece cuando hay cien millónes menos de euros de ingresos y cuando estamos hablando de presupuestos del año dos mil catorce dos mil quince dos mil dieciséis que han ido incrementándose o han seguido incrementándose mire

y responsable y estamos impulsando además no solo la reflexión sobre lo que está sucediendo si no la proactividad compartida conjunta en el ámbito de la administración pública institucional vasca desde el respeto al ámbito competencial y también teniendo en cuenta las limitaciones del contexto

e internacional en el que nos movemos vamos a seguir garantizando la estabilidad y la sostenibilidad vamos a seguir garantizando la política económica y los servicios públicos a la ciudadanía así lo hemos hecho estos últimos años y la situación y hoy la situación

que ayudarán además de con la acción de la política pública desde las administraciones públicas vascas en el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar o del sistema de protección también ayudará a la inversión el consumo el crecimiento y el empleo

que es lo que nosotros venimos diciendo también que es la mejor política social que podemos garantizar para los vascos y vascas en el futuro eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

en la reparación del eventual perjuicio que los hechos presuntamente delictivos

y se ajusta estrictamente al mandato adoptado por esta cámara

quince y ratificado ayer mismo literalmente que inste al gobierno y citó textualmente a emprender cuantas medidas sean necesarias para recuperar los fondos públicos concedidos por dicho gobierno respecto de los que una sentencia determine

está personado en dos procedimientos el procedimiento penal que se tramita ante el juzgado de instrucción número tres de vitoria

número uno de vitoria gasteiz y además el tribunal de cuentas tiene abiertas unas diligencias preliminares en relación con este asunto en la que también estamos presentes colaborando en la defensa de los intereses generales de la hacienda general del país vasco yo no veo

en ninguno de los procedimientos que justifique un cambio de criterio usted pregunta por las medidas adicionales que van a adoptar que se van a adoptar por parte del gobierno el gobierno tiene estas tres personaciones y hasta la fecha no se han producido datos nuevos que justifiquen un cambio de criterio o

ya la conocíamos es una suerte también el poder hacerle la pregunta directamente a usted ya que usted fue el máximo responsable de la negociación de aquellos presupuestos con el gobierno de zapatero con lo cual conocerá los temas negociados dos de los proyectos que

y el hiriko también negoció el tema de pasaia

colación de tras una denuncia del fiscal no sé si conocerá la señora arantza zenarruzabeitia aparece como imputado por su actuación en el caso

pero eso aquí no toca pero otro tema sí que toca y eso sí afecta a la actuación del gobierno que es el señor

que es el director de presupuestos del gobierno este señor está imputado por un tema de y leo textualmente facturas falsas desvíos de fondos públicos en beneficio de denokinn y por haber elegido a esa empresa a dedo para un proyecto

el señor hernando era el director de innovación y promoción económica de la diputación foral de álava y en el juzgado las pruebas que se han presentado aparecen emails que se enviaban entre

que estaban detrás del proyecto de denokinn en la diputación foral de álava

encausados con lo cual del tema sabe bastante

aquí con lo cual es más del pnv que seguramente o por lo menos tanto

el fiscal cursó la denuncia en diciembre del dos mil quince y ahora el juicio está en marcha su código ético o el código ético

dice una cosa tal cual la imputación de los cargos públicos o asimilados en cualquier proceso

derivada de hechos vinculados al ejercicio de sus funciones públicas de su cargo o por acciones de singular relevancia pública se elevarán a la comisión de ética pública para que emita la recomendación

se han hecho cargo ustedes de algo como gobierno existe esa recomendación

existe un cese de esta persona por estar imputada por delitos muy graves existe algún tipo de actuación por parte del gobierno ante esta persona no van a hacer nada va a seguir todo igual seguirán amparando y encubriendo

y es que se les junta absolutamente todo porque es que también hay solo hay que revisar las últimas noticias hay otra persona imputada en este caso no por la trama denokinn

han actuado ya existe la recomendación lo digo sinceramente porque no lo conozco existe esa recomendación no hay absolutamente nada ustedes se hacen cargo de ello no se hacen cargo creen que el gobierno no tiene por qué actuar en este caso ni ante ninguno de los imputados o de las personas imputadas que pertenecen a su gobierno porque nosotras y nosotros lo tendríamos bastante claro esas dos personas hoy

ya no estarían dónde están y si no es así se lo pedimos también haga uso de su responsabilidad hagan uso de sus responsabilidades

de corrupción sigan desempeñando una labor pública ustedes deben actuar y es momento de hacerlo ya y por eso le preguntamos van a hacer algo han hecho algo o esperan hacer algo

del resumen que me ha hecho de la lectura de los medios de comunicación de datos e informaciones publicadas recientemente en medios de comunicación escritos en las que se mencionan personas ajenas a esta administración y decisiones adoptadas no por este gobierno sino por instituciones forales o municipales

o de otros ámbitos territoriales en relación con

no hay ningún problema es que usted veo que lee la prensa y la resume bien pero es que en relación con las consultas formuladas por los altos cargos de este gobierno en relación con ese precepto del código ético que usted ha comentado hay numerosas

algunos especializados prácticamente en hacer un seguimiento en todas las resoluciones del código ético de la comisión ética perdón que se publican en la página web todas están públicas todas

y hay un seguimiento de los medios de comunicación y precisamente a propósito de la cuestión que plantea usted

formuladas por altos cargos que han sido invitados a declarar ante algunos jueces de instrucción en calidad de investigados en relación con eso hay ya una doctrina formulada por la comisión de ética pública que lleva ya más de un año y todas las resoluciones están ya publicadas usted entre en google sin más fácil

del conocimiento público que está hecha pública desde hace ya más de un año

en relación con lo que opina la comisión de ética a propósito de las declaraciones a citar

yo estoy abierto a lo que usted quiera comentar a propósito de esta cuestión ahora o en el futuro pero le invito que en primer lugar

y conozca exactamente qué es lo que se postula a este respecto eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

avanzar un buen plan de reciclaje de formación un sistema adecuado de horarios incluido el derecho al descanso y un sueldo justo

acogiéndolos como personal propio interpretando que son trabajadores de la administración vasca y equiparándoles a ellos en todos los efectos parece

veo y la realidad me indica que no es esa la actitud del departamento y no es esa la actitud que lleva a las reuniones le voy a dar ciertos hechos la equiparación salarial que solicitan los médicos forenses es establecimiento del nivel veintisiete punto dosb de la administración general

es un planteamiento lógico es un planteamiento oportuno es justo y además es presupuestariamente ridículo porque tiene una implicación presupuestaria insignificante

se han reunido en cuatro ocasiones y le digo cuatro reuniones exactamente para volver al principio para volver al inicio en esa última reunión

se dignó a acudir la viceconsejera el allí responsable señor arturo uriarte

la propuesta anterior de los médicos forenses que ya conocían aquella que premiaba a los altos cargos pero penalizaba a los médicos forenses generalistas

sería la primera huelga en el mundo que concluye con una mejora salarial para los jefes para los jefes que por supuesto no participan en la huelga sin embargo

incluso da un paso atrás retrotrayéndose precisamente a la primera reunión

que conllevaba bajarles los sueldos si no lo digo reviento

y su actitud es soberbia destructiva y no es digna de un representante gubernamental

parafraseándole señor erkoreka si no lo digo reviento no solo no es cuestión de sueldo digno sino que también todo lo que están diciendo en torno a la está lleno de imprecisiones

no se cree en el instituto porque es incompatible

diferenciados con respecto al personal de la administración vasca hay una iniciativa presentada porque este parlamento está

que se programe que el señor arieta araunabeña nos lo traiga a la comisión de instituciones para que lo podamos discutir y mandemos un mensaje claro al gobierno
de que atienda las reivindicaciones de ese colectivo eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

agentes nos repiten con insistencia que la gran asignatura pendiente de nuestro vino denominación de origen rioja de álava sigue siendo su promoción y reconocimiento en el mercado interior más cercano bizkaia y gipuzkoa de todo el vino denominación de origen rioja que se consume en bizkaia

señora consejera qué valoración hace del bajo conocimiento y consumo del vino de rioja alavesa
en bizkaia y gipuzkoa eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señora lópez de ocariz este tema viene siendo ya de debate y reflexión desde hace bastante tiempo

escuchó en las comparecencias de una serie de personas en la comisión pero realmente le voy a decir que no disponemos de datos concretos que avalen esas afirmaciones los únicos datos que tenemos en este momento son los del conjunto de euskadi luego vamos a partir de ahí pero por qué habla solamente de gipuzkoa y bizkaia acaso todo el vino que se bebe en álava es de rioja alavesa

pero bueno no le quepa a usted ninguna duda que como gobierno estamos emprendiendo las acciones correspondientes desde nuestra presencia en gastronómica en el basque fest en ardo koloreak

en todas aquellas actuaciones tanto locales como internacionales pero por muchas actuaciones sí quisiera reiterar un mensaje que para poder comercializar bien y diferenciar bien un determinado vino y que los consumidores sepan que están bebiendo y pidiendo vino de rioja alavesa hay que poderlo hacer y en este momento como usted bien sabe

porque a pesar de todos los intentos que hemos hecho todo el sector vitivinícola y desde luego por parte del gobierno porque la denominación de origen rioja

eso a día de hoy es imposible y lo que nos está pidiendo el sector es precisamente eso que se pueda diferenciar claramente el vino de rioja alavesa y no tanto

pero solo con la promoción si realmente luego no lo podemos diferenciar flaco favor hacemos al sector

del vino de rioja alavesa hace hoy mismo pero también hace pocos

de comunicación brindaremos con vino de rioja alavesa para el final de la legislatura y usted contestó

otra cosa será que rioja alavesa aparezca en el etiquetado de la botella que nos bebemos yo le voy a no mire yo tengo una etiqueta de un vino

pero es que hay más de ciento cinco bodegas en rioja alavesa que etiquetan así eso también nos dijo abra en la comisión por lo tanto señora consejera usted no se ajusta a la verdad no se ajusta a la verdad

o es otra cosa es hacer política a costa del vino de rioja alavesa eso es lo que hace usted menospreciando el vino de rioja alavesa

soy optimista lo vamos a conseguir lo estamos intentando y está sobre la mesa

qué es personas influyentes mire la única mesa influyente es la mesa del consejo regulador de la denominación de origen rioja así se lo dijo el comisario a la señora bilbao en bruselas así se lo dijo por lo tanto señora consejera ajústese a la verdad flaco favor le hace usted al vino de rioja alavesa hemos tenido aquí años sentado

agricultura productor de vino de rioja alavesa nunca

nunca y vienen ustedes a darnos clases de qué de qué hacer política a costa del sector primario señora consejera respeto para el vino de rioja alavesa respeto

ciento cinco bodegas de abra tienen este etiquetado ciento cinco bodegas

que pide que de forma interna se mejore la visibilidad de la etiqueta de las zonas

interna no en los medios de comunicación hablando falsedades señora consejera porque usted dice falsedades aquí lo ha dicho que no se puede diferenciar señora consejera qué le parece a usted no ve que pone rioja alavesa lo ve o le regalamos unas lupas si usted no ha bebido vino que en la etiqueta ponga rioja alavesa es

o porque como le he dicho utiliza el sector primario con fines partidistas

eso no favorece al vino de rioja alavesa señora consejera eskerrik asko lópez de ocariz andrea jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza

no esté usted tan enfadada por una cosa que es real si algo está pidiendo el sector vitivinícola de rioja alavesa es que se diferencie

y desde luego si algo pide abra además de todo eso es que se haga de una manera clara y que si no se puede hacer y usted lo sabe perfectamente como lo hemos intentado durante mucho tiempo y estoy segura de que y miraba usted ahí porque se sentaba ahí efectivamente el señor si no se puede hacer en este

pueda articular otras medidas que permitan que el vino de rioja alavesa quede claramente diferenciado por su calidad por su forma de trabajar y por su característica respecto al vino de

es la comunidad de la y usted lo sabe perfectamente pero no lo digo yo lo dicen los bodegueros lo dicen los agricultores la necesidad de articular un modelo específico al que la denominación de origen se niega absolutamente

con el vino y con el sector vitivinícola permíteme que se lo diga es la denominación de origen donde realmente las personas influyentes son

sector influyente como es el vino y como es el sector vitivinícola alavés esos son los influyentes para nosotros si alguien está haciendo política desde luego para su ámbito es usted y lo sabe perfectamente porque no quieren bajo ningún concepto que esa diferenciación sea clara y definida pero dígalo claramente porque eso es lo que no quiere eskerrik asko

egun on guztioi señora consejera hoy vengo a preguntarle por el coche eléctrico pero no se asuste ya habrá leído la pregunta y sabrá que no me refiero a un tema de permanente actualidad en este parlamento

a un coche eléctrico de los que andan y de los que funcionan y de los que tienen futuro modan dago gai hau mundu mailan eta egia da

proyecto que es solo fase de consideración por parte de la propia empresa no queremos aquí hacer la versión vasca de bienvenido mister marshall ni las cuentas de las lechera no vamos a hacer el ongi etorri

y por remota que sea esa posibilidad merece la pena analizarla y merece la pena que exista un dossier en el cual se pongan en valor

también para otras empresas pero con una consideración específica a las necesidades que pueda tener tesla en el caso de que considere implantar esta

en los países bajos en una fase de ensamblaje pero es cierto que se prevé

en europa una mayor demanda y por tanto pueda reconsiderar la cuestión de su implantación nosotros evidentemente creemos que es una cuestión que hay que estudiar

hay que analizar muy bien la oferta pero también nos gustaría que existiera desde ya

con las posibilidades que ofrece para la instalación de una factoría de estas características

hacer una propuesta de este nivel y por tanto creemos que hay que seguir trabajando creemos que hay que redondear la propuesta

para estar encima de la mesa de quien tenga que tomar la decisión eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea estoy plenamente de acuerdo con lo que usted dice por tanto

esa propuesta y también le adelanto que el clúster de automoción acicae va a estar en california en junio precisamente para conocer de primera mano las posibilidades hacer una primera presentación de cuáles son las opciones de euskadi de qué podemos ofrecer en qué condiciones y analizar insisto de primera mano qué es lo que cuáles son las posibilidades

pero no va a ser solamente en este caso en el caso de tesla como le decía sino que pretendemos que eso mismo lo podamos ofrecer a otros posibles proveedores analizando cuáles son nuestras fortalezas en la cadena de valor y dónde están las mayores dificultades que normalmente están ligadas

vamos a decir cómo conseguimos almacenar la energía en el ámbito de innovación estamos

una oferta completa pero sin duda continuaremos trabajando tal como lo hemos hecho hasta ahora porque consideramos que

de productores importantes y vendedores importantes comercializadores como volkswagen mercedes o tesla son el camino que tenemos que seguir a partir de ahora eskerrik asko

gracias presidenta buenos días

bueno consejero la razón por la que planteo una interpelación es básicamente porque

hablar atropelladamente en el tiempo breve de una pregunta oral pero espero que me sobre tiempo incluso es más confío en que la respuesta va a ser satisfactoria y que no será necesario

bueno conoce seguramente ya los términos de la cuestión y la justificábamos diciendo como el gobierno en la página de irekia

en enero de este año colgó el borrador de decreto el borrador de decreto sobre el derecho subjetivo en fin

quejas a raíz de eso el grupo parlamentario socialista presentó una iniciativa que se llegó a acuerdo el catorce de abril en un transacción con upyd

decíamos entre otras cosas que se mantuviera el criterio existente sobre las condiciones de acceso al derecho subjetivo decíamos concretamente

bueno que fuera el sistema que se sigue con la pcv usted

en estos términos usted sabe que el departamento de empleo y políticas sociales comenzó la elaboración del decreto de desarrollo desde la entrada en vigor de la ley de vivienda

señor itxaso publicar el borrador no fue afortunado fue un ejercicio de transparencia pero podíamos haberlo evitado bueno el caso es que

por otra parte pues en fin hay que agradecer por su franqueza y por lo sincero de la misma pero es que tres días después de estas declaraciones el veintitrés de mayo en el portal

entre los documentos que aparecen aparece un nuevo borrador de decreto que hemos comparado con el anterior y efectivamente no presenta diferencias sustanciales y mantiene

los criterios de acceso más restrictivos de las dos opciones que se venían planteando por eso aunque yo espero que la respuesta sea satisfactoria tengo que formularle la pregunta

ese acuerdo del catorce de abril que tiene una serie de puntos pero que básicamente en lo que nos concierne habla de mantener el criterio anterior

elaborando con el mayor consenso posible un decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada que evite el endurecimiento del acceso a las ayudas para el pago de alquiler en euskadi bueno esta es la cuestión realmente no da lugar tampoco a muchas disquisiciones quiero pensar que la voluntad del gobierno es hacerlo en esos términos y que el reconocimiento o confesión que hizo en su día tiende a

un borrador diferente al que hemos visto estos días en este portal eskerrik asko

ematen da tenemos dos dificultades para desarrollar bien este proyecto en primer lugar

empiezo por aquí para mostrarle nuestra voluntad de hacer un desarrollo sea fruto del consenso de todos o casi todos los miembros de esta cámara en primer lugar

solo en el artículo creo que es el nueve toda vez que únicamente se regulan los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias

a un desarrollo posterior que es el que después hay que hacer complejamente

no ha regulado cuestiones tan fundamentales como cuál es la cuantía de la ayuda que luego afortunadamente se reguló en la ley de presupuestos

en qué momento se produce el devengo y en qué momento el pago cuál es la duración del derecho cómo se realizan las revisiones periódicas cómo se extingue el derecho no me voy a extender más

al definirse la prestación complementaria de vivienda en la ley de inclusión social sin embargo la ley de vivienda omitió cualquier elemento que configurara de manera suficiente este derecho subjetivo de ahí pues la complejidad que usted puede entender

que dificulta el desarrollo reglamentario de este derecho subjetivo es una falta importante de medidas que hagan posible la integración de las dos ayudas destinadas

actualmente tiene carácter de derecho subjetivo antes no lo tenía y eso hay cuestiones que lo modifican sustancialmente y hay también leyes básicas que nos limitan cosa que antes no nos limitaban la prestación complementaria de vivienda derivada del sistema de inclusión social y la nueva prestación económica de vivienda

esta dificultad de integrar ambos sistemas a los que me refiero y me he referido en numerosas ocasiones ha sido advertido no solo por este departamento sino por todos ustedes y por todos los grupos parlamentarios representantes en esta cámara en los distintos debates y preguntas

de celebrar después de la aprobación de la ley desde su punto de vista esta falta de regulación podrá ser considerada como una ventaja para el ejecutivo a la hora de desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda sin embargo desde nuestro punto de vista se ha trasladado

que a nuestro juicio deberían haber sido tomadas por el legislador por esta cámara durante la tramitación de la ley de vivienda

y solo de esta manera podría entenderse algunas de las propuestas aprobadas en aquella proposición no de ley del pasado

en primer lugar en aquella proposición se instaba al gobierno a respetar el espíritu de la ley

es la literalidad de la norma aprobada sin que haya mucho margen para hacer interpretaciones subjetivas se lo dije entonces voluntas legis

y voluntas legislatoris la voluntad del legislador o mejor dicho la voluntad de lo que dice que quiso decir el legislador lo cual empieza a liarnos artículo tres del código civil pero bueno haremos lo que esté en manos de todos sin

en todo caso modificándola pero no saltándola en segundo lugar se instaba al gobierno vasco en aquella proposición a garantizar que el ejercicio del derecho subjetivo en su modalidad de prestación económica no supusiera ni en requisitos ni en cuantías ningún recorte en los derechos anteriormente reconocidos además

y de la nueva prestación económica no la mera sustitución de una por otra este aspecto es muy

que dirijo ha mantenido los dos sistemas vigentes en tanto en cuanto no exista consenso suficiente sobre cómo integrar ambas ayudas destinadas al pago de alquiler de una vivienda y señores parlamentarios señor itxaso este gobierno va a hacer lo posible para que el desarrollo reglamentario de esta ley lleve el proceso que tenga que llevar

excluida de los sistemas de protección social con los que nos hemos dotado

gobierno y en este país en tercer lugar en aquella proposición se instaba al gobierno

en la adjudicación de las viviendas pertenecientes al parque público de alquiler del gobierno vasco bueno tengo que decir que esta medida viene siendo ya aplicada

en cuarto lugar aquella proposición instaba al gobierno a que el decreto de desarrollo estableciese tres años como antigüedad máxima en la condición de demandante exclusivo de alquiler en el registro de solicitantes de vivienda protegida y alojamientos

que se especifican en la disposición transitoria cuarta de la ley claro es sorprendente y lo digo

sin querer ofender ni mucho menos a nadie que sea ahora el legislador quien solicite

que establezca un requisito que pudo haber regulado anteriormente la propia cámara por qué en la proposición de ley presentada por el grupo socialista no se incluyó de manera

y no cuatro yo ya lo dije en otra ocasión

con el decreto esto no lo vamos a poder cambiar esto no finalmente solicitaban al gobierno vasco que en ningún caso los requisitos sobre las rentas exigibles a los beneficiarios subjetivos de la vivienda

para la obtención de la renta de garantía de ingresos itxaso jauna no ha pasado un año desde la aprobación de la ley de vivienda

indefiniciones de las que adolece así como de los continuos intentos por parte de su grupo parlamentario y también del

bildu que aprobó esta ley de intentar hacer responsable al gobierno vasco de las decisiones que ustedes mismos no adoptaron y que ahora estamos tratando de sacar adelante y esto nos plantea a nosotros dificultades

para gestionar este compromiso con los colectivos más vulnerables para que no queden afectados que es el fin que creo que compartimos todos los que componemos esta cámara empezando evidentemente

por el grupo parlamentario que sustenta este gobierno eskerrik asko toña jauna

sí que se han escuchado con anterioridad a quienes impulsamos y llevamos adelante el acuerdo de llevar la ley en los términos en los que está y a lo largo de este proceso

de que no gustaba no gustaba la determinación y la vocación que inspiraba la ley no gustaba al gobierno

si la ley hubiera recogido todos los aspectos atinentes de los cuales usted solo ha dado una muestra pues en vez de una ley igual habríamos tenido que hacer un código

la ley de la manera más sucinta de la manera más lacónica si cabe aunando voluntades diversas y planteamientos políticos e ideológicos incluso distintos trata de buscar un consenso y un lugar común

en este caso tienen que ver con el derecho a la vivienda cuando voluntariamente se deja un amplio espacio de regulación al gobierno

en fin áspera pero que al gobierno le faculta y le permite precisamente dentro de sus

encontrar las mejores opciones de las posibles acordes con el espíritu de la ley lo que pasa es que intuía también

iba a ampararse en esa tarea reglamentaria para esbozar dificultades de todo tenor

no presentó enmienda alguna a esta cuestión de los plazos y demás y hubo posibilidades de tratar sobre ello porque nosotros teníamos una enmienda pese a ser los proponentes hicimos con posterioridad dos enmiendas

en fin sin más ni más solo por el hecho

pero como eso resultaba bastante maximalista nosotros mismos dejamos

enmienda en esos términos porque entendemos la dificultad pero lo que no nos convence señor consejero es que dentro de las dificultades que pueda tener el gobierno para poner a velocidad de crucero la ley

porque claro la interpretación literal bueno no sé si será pedante también pero creo que algunos de los aquí presentes representamos la interpretación auténtica de esa ley y desde luego en ningún momento la vocación de la misma grupos que la auspiciaron fue menoscabar o reducir las condiciones de acceso a los derechos preexistentes derechos subjetivos también y como resulta que de la presentación de borradores de decretos es decir ni siquiera han constituido

definitiva sino que han sido amagos han sido meras presentaciones han creado ya

algunas quejas importantes y algunas alarmas en colectivos sociales y desde luego en los grupos que auspiciamos la ley y por eso es por lo que le preguntamos señor consejero sobre todo por la voluntad

jurídico porque el derecho es como las navajas suizas decía alguno tienen múltiples posibilidades de uso y desde luego con el tenor literal de la ley hemos dicho anteriormente y volvemos a repetir el gobierno no debiera de tener problemas para reglamentar

lo que yo le pido señor consejero es que nos exprese la voluntad del gobierno si es mantener las condiciones de acceso

monetariza el derecho a la vivienda en este caso en los términos en los que ya está

a endurecer las condiciones de acceso aspecto que nosotros rechazamos es por esto por lo que le preguntamos señor consejero por la voluntad del gobierno

mire señor itxaso empiezo por el final si

hubiese sido torticera el decreto estaría aprobado en unos términos que seguramente

que con los ritmos y el tiempo que nos tenemos que tomar para consensuar los términos del decreto será bastante razonable pensar que el decreto no va a estar aprobado en esta legislatura y afortunadamente

tiempo transitorio durante el cual estarán vigentes

un tiempo transitorio que no puede ser eterno pero el tiempo suficiente que necesitemos para alcanzar consensos razonables que no perjudiquen a nuestros ciudadanos

se inició el veintinueve de diciembre de dos mil quince usted dice que se deja un amplio espacio al gobierno

ya pero cuando se aprobó la ley no se dio un amplio espacio al grupo parlamentario nacionalista para que sumase a la aprobación de la ley se aprobó rápidamente sin darle

posteriormente fue necesario introducir mejoras y modificaciones en el texto realizar el necesario contraste a nivel interno por el que efectivamente el nuevo texto fue recientemente incluido tanto en legegunea como usted ha dicho como en la plataforma de transparencia del gobierno vasco

desde que se conoció el primer borrador del decreto de desarrollo del derecho subjetivo han sido numerosos los agentes y asociaciones que se han trasladado que han trasladado a este departamento entiendo que también a los grupos parlamentarios sus consideraciones no solo sobre el contenido del decreto

y es por ello que nosotros en el departamento hemos considerado oportuno continuar con la tramitación del decreto para abrir la fase de audiencia y poder recoger por escrito y de manera oficial las propuestas de los agentes afectados por este derecho subjetivo hemos notificado el proyecto de decreto a los ayuntamientos más importantes y a las diputaciones forales y a eudel se ha remitido la notificación correspondiente a las asociaciones los sindicatos

aunque fuera de manera informal o verbal sus opiniones y consideraciones sobre el derecho subjetivo en concreto nos hemos dirigido a elkartean a eapn euskadi a la red europea de lucha contra la pobreza

a argilan a berri otxoa y en todo caso como puede ser de otra manera si se pusiera en contacto con el departamento otros organismos agentes o sindicatos se les notificaría igualmente el texto

hemos dado un plazo mayor que el que legalmente está establecido para que puedan remitir sus aportaciones y no nos negaremos a ampliar en los plazos si son necesarios

que es necesario un plazo superior para realizar un estudio adecuado del texto y para finalizar le tengo que decir señor itxaso que desde el departamento reiteramos que ante las dificultades actuales para integrar los dos sistemas de ayudas para facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler

se encuentra en estos momentos desprotegida y no es voluntad de este gobierno dejarla desprotegida faltaría más el derecho es verdad que es interpretable pero

las autoridades y los procedimientos que tenemos que pasar para que un decreto finalmente sea aprobado por lo tanto las personas que podrían acceder

de vivienda se van a ir sumando poco a poco las personas beneficiarias de derecho subjetivo

la aprobación del decreto pues hoy estaríamos en peor situación mejor tomarnos el tiempo que necesitemos es necesario creo un consenso para realizar una adecuada integración de los dos sistemas pero mientras se llegue a este consenso es obligación de este gobierno desarrollar este nuevo derecho subjetivo para dotarnos de una mayor garantía y seguridad jurídica para que las personas beneficiarias también lo conozcan y sin que ello les perjudique ni a las personas que son actualmente perceptoras de la prestación complementaria ni a quienes vayan a serlo

lo que la legislación nos obliga y nos mandata cumplir

aginduak arautzen ditu la orden del entonces consejero de vivienda a la que nos estamos refiriendo del quince de octubre del dos mil doce en sus artículos nueve y diez

dicho de otra manera se deja fuera unos colectivos concretos entre los cuales se encuentran personas en situación vulnerable delicada de verdadera necesidad por un parte están las personas con una vivienda en propiedad

o de divorcio y nos preocupan especialmente las mujeres víctimas de violencia machista que tienen que salir con urgencia de su domicilio y por tanto no podrán inscribirse hasta poseer una sentencia

por otro lado personas que aunque tengan una vivienda en propiedad están inmersas en un proceso de desahucio y que no podrán inscribirse en ese registro hasta que esa vivienda se adjudique

por otra parte también están las personas con una vivienda en propiedad que se han visto obligadas a abandonar su casa aunque sea por causa de fuerza mayor incluidas las personas y familias que tienen que abandonar su domicilio por una catástrofe natural y también nos preocupan y mucho

irregular porque no tienen la autorización de residencia en vigor es decir este grupo de personas en concreto que de por sí ya

tienen también seria dificultades cuando no le resulta imposible culminar

por su procedencia o por su situación administrativa

eh bildu también lo recordará usted a través de una iniciativa propia puso en valor

está claro y demostrado que aportan mucho más de lo que reciben

lo que reciben precisamente son o recortes o dificultades para acceder al sistema o campañas

por el mero hecho de haber nacido en otro lugar vamos a ver si somos capaces de hacer que este colectivo reciba cada vez menos palos y reciba

adjudikazioa ere arautzen dela se ha referido usted señora blanco a otros colectivos aunque es verdad que el colectivo más importante es de los colectivos de irregulares el de los extranjeros

aportan mucho más de lo que algunos colectivos quieren decirnos que nos quitan

orden que regula la inscripción registros de solicitudes y en concreto

los requisitos y excepciones a estos y los requisitos de las personas extranjeras y en relación a las personas extranjeras el artículo diez de la orden que hemos dicho que hemos citado determina los requisitos exigidos para su acceso al registro de solicitantes de vivienda siendo el primero de ellos el de estar en posesión de una autorización de residencia en vigor a ello me referiré más adelante

a los derechos de las personas extranjeras en el estado y la evolución a peor que ha sufrido en la misma en los últimos dieciséis años y le anticipo que supongo y supongo bastante bien nuestro grupo parlamentario en el congreso de los diputados estará en condiciones de que si se dan las condiciones y se solicita modificar algunas de las

a los derechos de los extranjeros y de los inmigrantes lo votará y lo valorará muy positivamente

entre tanto nosotros cumpliremos la normativa que está en vigor y que

ni vamos a ser desobedientes en estas cuestiones creo que el rigor institucional y el rigor del cumplimiento legal es una característica

que fuese propia de este parlamento que creo que lo es sinceramente en su primera redacción el artículo trece al que me refiero relativo a los derechos en materia de vivienda

en materia de vivienda en las mismas condiciones es decir las personas que se encontraban en situación irregular pero figuraban inscritas en el padrón municipal tenían derecho a acceder al sistema público pero es importante reseñar que a tenor de lo establecido en la propia ley orgánica había que entender como situación irregular

o tener caducada más de tres meses la autorización siempre que no se hubiese solicitado

solo unos meses después en diciembre del dos mil se modificó el artículo diez omitiéndose la referencia relativa a las personas extranjeras que se encontraban inscritas en el padrón municipal

quedaba vinculado a la obtención de la residencia temporal o de larga duración con los recortes serios recortes que nos obligan

la última modificación se produjo en elaño dos mil nueve y en ella se equipara el derecho al acceso al sistema público de ayudas en materia de vivienda a las personas extranjeras residentes

por lo tanto la conclusión que debe extraerse es que en el momento de ejercitar la competencia normativa para regular el acceso al sistema público de vivienda vasco tenemos obligación de respetar los principios establecidos en la referida ley orgánica nos guste o no guste lo digo por activa y por pasiva

y alojamientos dotacionales cumple con lo estipulado en aquella ley no podía ser de otra manera por otro lado la decisión de introducir dichos requisitos se tomó como consecuencia de la necesidad de abordar la cuestión de referencia que estaba ocasionando

en este punto me gustaría destacar además que para establecer la nueva regulación se contó con el asesoramiento específico del servicio vasco de integración

vinculado a la dirección de inmigración del gobierno vasco que también evidentemente contra seguramente su voluntad tuvo que respetar la ley orgánica que es una ley de bases

una contradicción por un lado tenía que adjudicarse una vivienda de protección oficial cuya principal característica reside en la utilización de la misma como domicilio habitual tal como lo establece el decreto treinta y nueve barra dos mil ocho sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública

lado dichas personas no tenían permiso de residencia permiso que otorga otra administración en este caso la estatal tal y como le hemos señalado anteriormente no obstante hay que decir que la actuación del gobierno vasco ha ido más allá de lo estipulado en la ley orgánica

para su inscripción la posesión de una autorización de residencia en vigor pero se posibilita a las personas extranjeras con autorización temporal que se inscriban en el registro de solicitantes

en régimen de arrendamiento no en régimen de compra y por lo tanto la orden de quince de octubre de dos mil doce otorga una mayor protección dentro del cumplimiento de la ley de bases de la ley orgánica a las personas extranjeras

trece de la ley orgánica estatal eskerrik asko eskerrik asko toña jauna blanco andrea zurea da hitza

konponbide bat bilatzea hori hasteko hablábamos usted también decía que ese colectivo precisamente es el más amplio el que se encuentra

de otros colectivos porque están pasando además por situaciones de verdaderamente dificultosas o penosas hablábamos de mujeres víctimas de violencia

personas que han perdido su vivienda por una catástrofe natural por un incendio por una inundación

y que ahora mismo están discriminadas y discriminados a la hora de acceder a una vivienda y a la hora de recibir esta prestación

bueno usted dice que esa orden no se puede modificar y ha hecho referencia a leyes orgánicas ha hecho referencia a cómo está la legislación en el estado español y usted mejor que nadie sabe que nosotros y nosotras hacemos la misma lectura que usted hace con respecto a las leyes en el estado español

desde aquí y creo que no nos podemos escudar en eso para no modificar la orden porque si la orden

esa orden se puede modificar para hacer restricciones por qué no se puede volver a modificar para dejar sin efecto esas restricciones y esos recortes eso es lo que nos preguntamos por lo tanto pensamos que algo desde luego sí podemos hacer y competencia desde luego tenemos en esa materia para poder terminar con esa situación que no está más que discriminando a colectivos que ya están bastante discriminados

porque ese colectivo mayoritario esas personas que se encuentran en situación administrativa

además tienen que soportar o se encuentran con otras situaciones realmente injustas recordemos que ya han visto recortados sus derechos en el acceso a la salud que han tenido que soportar discursos xenófobos por intereses electorales como le decía en el primer turno

no tenemos más que recordar la situación de algunos centros educativos en gasteiz

están en el punto de mira y no podemos darles la espalda para nosotros y para nosotras son personas vascos y vascas que han venido aquí a labrarse un futuro y a intentar vivir dignamente y si algo tan básico como una vivienda digna no se la podemos garantizar pues desde luego su inclusión va a ser realmente complicada

explícito y comparte ese diagnóstico que nosotros y nosotras hacemos si comparte que ese colectivo realmente está viviendo una situación discriminatoria y después más que escudarse en lo que está ocurriendo en el gobierno en el estado español a ver si somos capaces de buscar una solución para este colectivo y se lo hemos dicho en muchas ocasiones

aproveche señor consejero que en este caso no tiene de su lado y nos tiene a su lado eskerrik asko

dela este derecho subjetivo se puede satisfacer de dos maneras de manera preferentes a través

dotacional en alquiler y subsidiariamente y ahora vamos a hacer una

a través de la prestación económica yo he dicho que la orden de dos mil doce la hemos estirado se estiró en su día también en lo que se

aceptando la residencia temporal para solicitar vivienda en alquiler

podemos hacer es ignorarla no me escudo

en las leyes españolas pero cuando tengo que cumplirlas las tengo que cumplir y punto otra cosa es

pero le voy a hacer una distinción muy importante que yo no sé si somos todavía muy conscientes la ley de inclusión de dos mil ocho que contemplaba la prestación complementaria de vivienda

una prestación económica de vivienda que es lo que nos pasa que aquí sí nos entra en vigor plenamente las leyes

y por lo tanto nos afectan seriamente un derecho subjetivo a la vivienda

exige por mandato de ley orgánica residencia temporal o de larga duración o definitiva pero

no permite el mero empadronamiento y esto me lo tiene que entender usted señora blanco cómo no me lo va a entender

inor utzi gabe de todos modos esta interpelación que hoy ha realizado aquí a mi juicio debía haberse realizado no ahora sino también

de la ley de vivienda me lo tiene que reconocer trabajaremos juntos

pero hubiese sido bueno conseguirlos antes ahora quizás es posible pero me tiene que reconocer que ahora es más complicado porque ahora quizás

leyes que si no se hubiesen aprobado de aquella manera ahora no tendríamos estos problemas eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios consejeras y consejeros buenos días

sus proyectos de ley y eso es una crítica pero no es la que queremos efectuar ahora o sobre lo que queremos que se nos responda ahora la el proyecto de ley de patrimonio documental y sistema de archivos de euskadi se está viendo en esta cámara

las comparecencias de los expertos o se las habrán contado pero las comparecencias ante la comisión de cultura del parlamento vasco en relación con la tramitación de este proyecto ley de patrimonio documental y sistema de archivos de euskadi

no sería la ley que necesita euskadi para la gestión de estas materias importantes es decir la presencia en comisión de determinados expertos y colectivos que los agrupan han puesto sobre la mesa y aportado datos sobre las insuficiencias las contradicciones las carencias que tiene este proyecto de ley

la posibilidad de ser completado en un análisis de enmienda o en un trabajo de ponencia también fundamentalmente por el tiempo es un proyecto defectuoso desde la base que lo han constatado

es decir deficiencias varias yo le pregunto cómo valora la señora consejera la opinión negativa del conjunto de expertos en relación con el proyecto ley
de patrimonio documental y archivos de euskadi eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

señor barrio todo en esta vida es susceptible de mejora

más adecuado para garantizar la gestión y conservación del patrimonio documental de euskadi y

por tres principios rectores búsqueda de la máxima eficacia en el ámbito normativo respeto escrupuloso del reparto competencial con el estado los territorios históricos y la administración local

señor barrio todas las aportaciones reflexiones y sugerencias son positivas y el debate enriquecedor

lo importante es que el texto resultante de todo este proceso responda a la realidad y necesidades actuales y nosotros entendemos que así es al menos en nuestro ámbito competencial

proteger conservar y difundir el patrimonio documental de euskadi articular el sistema de archivos de euskadi y favorecer el acceso de la ciudadanía a la documentación

gracias presidenta gracias consejera a nosotros nos han dicho que este proyecto de ley no es el adecuado

los máximos expertos en este país

miembros de la asociación que reúne a los archiveros

de este país responsables de archivos históricos provinciales nos lo han dicho responsables del gobierno vasco

más de treinta y cinco años en archivos en bibliotecas y en documentación y nos han dicho que si pudieran

retirarían la ley nos lo han dicho y no solo nos lo han dicho porque puede decir

nos lo han explicado señora consejera nos lo han explicado

le iba a preguntar en este segundo turno si se había planteado retirar la ley

pero si no se lo plantea igual le tendremos que ayudar porque está bien claro señora consejera que este proyecto de ley no lo han madurado suficientemente y es que además

nos hemos dado cuenta pero es que los aspectos negativos que nos han explicado afectan a todo aspectos negativos respecto a su objeto

por contradictorios aspectos negativos respecto al ámbito de aplicación de la ley no aclara el panorama actual

respecto a documentos y gestión documental respecto al patrimonio documental de titularidad privada respecto a los instrumentos respecto a los sistemas de archivos y a la coordinación respecto a la administración electrónica

y a renglón seguido nos han dado propuestas es decir estúdiese las propuestas y retire este proyecto de ley muchas gracias

eta ez dela lege honen bidez arautu behar horren eskuduntzen eremua gainditzen duelako el segundo aspecto es el relacionado con el valor permanente del patrimonio documental en ese sentido he de decir que al contrario de lo que se ha transmitido en alguna de las comparecencias

este ofrece una mayor garantía al patrimonio documental y garantiza el acceso del mismo eta azkenik

también tienen en su mano como ya le he dicho el poder llamar a comparecencia también en comisión tanto

están ustedes en su derecho en todo caso señor barrio como usted sabe hay también numerosos puntos de consenso por ejemplo también subrayó en su comparecencia

el hecho de reforzar el concepto de patrimonio documental el régimen sancionador

son aspectos que la asociación señaló como positivos de la ley en definitiva señor barrio considero que ustedes tienen un buen proyecto

y una buena oportunidad para que con las aportaciones y mejoras que aún se puedan realizar
euskadi cuente al fin con la ley de patrimonio documental y sistema de archivos que merece y necesita eskerrik asko uriarte andrea

aurka borrokatuz el pasado cuatro de febrero del dos mil dieciséis el tribunal supremo de florida decidió anular la culpabilidad de ibar y por tanto su condena a muerte

porque no disfrutó de su derecho constitucionalmente reconocido a una defensa letrada eficaz el pasado dieciséis de mayo del dos mil dieciséis

en tiempo informa por el estado de florida por lo que la decisión de cuatro de febrero del dos mil dieciséis

se congratula de estas últimas novedades pero no puede dejar de constatar que ahora pablo ibar se enfrenta a un nuevo juicio en el que puede afrontar

en virtud de lo anterior el parlamento vasco acuerda la siguiente declaración institucional bat

por ser una forma de castigo discriminatoria inhumana irrevocable y una forma de

de los derechos humanos y se ratifican en el rechazo a la pena capital

que ha expresado pública y continuamente su defensa del derecho a la vida

las leyes penales deben servir para reinsertar en la sociedad a quienes cometan delitos y no solo como simple munición hiru el parlamento vasco se posiciona a favor de la lucha

asociaciones no gubernamentales y activistas de los derechos humanos a favor de la desaparición de la pena capital en todos lo países

ello en el convencimiento común de que la pena de muerte viola el derecho fundamental a la vida de todas las personas lau